egongo zena precisamente ante este tratamiento segmentado que se les ha ofrecido a víctimas del franquismo dependiendo del decreto

sufrieron la vulneración esta ley que llamamos integral entendíamos que debía enfrentar en su globalidad

las víctimas del franquismo a cualquier víctima entre mil novecientos treinta y seis y mil novecientos setenta y ocho es decir

la guerra y la posterior dictadura franquista la estructura de esta ley consta de cuatro capítulos uno dedicado al derecho a conocer la verdad otro al derecho al reconocimiento y la reparación otro

de la verdad y se instituye el derecho a la justicia y por último el derecho a la memoria y garantías de no repetición creo que nadie puede poner pegas

además desde un planteamiento de contexto más amplio de un debate más amplio

y que busca la manera de superar los preceptos de la ley de amnistía y que implique además la aplicación de la convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra

traíamos esta proposición una proposición de ley que entendíamos abría el debate entre todos sinceramente pensaba que este texto habilitaba el inicio de una discusión legislativa asumía discrepancias cómo no asumía desencuentros desacuerdos

que se retire la propuesta que traemos de un manotazo creía que no había una razón para que esta iniciativa no fuera ni tan siquiera discutida aunque fuera por una cuestión puramente estética pero

en base a la opinión que ha emitido el gobierno contraria a la toma de consideración con dos argumentos que desde mi punto de vista son fácilmente rebatibles

porque sí que tomamos en consideración esta ley la tenemos en cuenta y es más dotamos a gogora de funciones más amplias para realizar su cometido concretamente en el ámbito de la investigación porque tiene un encaje además en el artículo cuatro punto tresc que habla

expresa la función de investigación promoviendo la investigación y colaborando con las instituciones entidades especializadas y foros de reflexión

mediante trabajos de investigación y estudio es esto lo que estamos solicitando que se haga por medio de esta ley que gogora investigue que establezca

las infraestructuras de documentación necesarias que recoja información que recoja datos verídicos para que

después una comisión de la verdad pueda emitir un dictamen que

que dote a las víctimas de reconocimiento y de reparación por lo tanto no solamente estamos en los parámetros de esta ley de creación de gogora entendemos que con esta ley lo que hacíamos era dotar de profundidad desarrollar esas capacidades

el segundo argumento que se nos planteaba es que no se puede acometer esta iniciativa desconociendo la intensa labor desarrollado durante los últimos años desde el gobierno vasco y el resto de las instituciones públicas de la comunidad autónoma en todas y subrayo todas

esta ley desconoce todas en todas sus áreas de actuación las iniciativas que se han estado implementando y a mí me parece

conozco la labor desarrollada por las instituciones por el gobierno vasco y otras instituciones públicas porque participo habitualmente en ellas y se me podrá reprochar muchas cosas pero no es desconocimiento porque no es solo conozco lo que se está haciendo sino que en muchos casos también lo reconozco se me

reprochar también que soy crítico con alguna de estas iniciativas pero entiendo que se están haciendo actividades

dependen de la buena voluntad de quien las diseña entiendo que son

que hoy tal vez se desarrolla porque hay un interés para hacerlo pero si mañana cambia la voluntad o cambia el interés puede variar y por lo tanto

prioritario era que esas medidas que ahora se realizan tuvieran un respaldo legal tuvieran un acomodo legal

tuvieran un respaldo y una imperatividad que solo la ley procurar y esos dos son los argumentos y con esos dos argumentos echa para atrás todo el debate legislativo una argumentación parca y desde mi punto de vista poco consistente tendremos debate y

me explican estos argumentos por los que presuntamente me salto no solamente las normas sino también la práctica y es precisamente lo contrario es ajustarse

no prosperará mi propuesta pero sí parece que planteará una contrapropuesta que se podría expresar de la siguiente manera rechazamos

va a respaldar la iniciativa la proposición de ley de memoria histórica para el reconocimiento y reparación integral de las víctimas del franquismo que trae hoy el grupo eh bildu porque consideramos que es necesario contar más completa e integral que la que existe en estos momentos respecto a una materia que es tan sensible y por lo tanto nos parecía que era pertinente

de hecho mi grupo trabajaba también para presentar una proposición de ley de memoria democrática desde el día en que esta cámara lamentablemente

aquella proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas de la dictadura que mi grupo trajo a la cámara a nuestro grupo desde luego no nos importa

lo importante para nosotros es que la proposición de ley está aquí y es una oportunidad para iniciar el trámite y trabajar una ley que consideramos necesaria

porque vivimos en un país que sufrió un cruento levantamiento armado contra la legalidad democrática que desencadenó en una terrible guerra y que instauró finalmente una ilegitima dictadura durante cuarenta años una dictadura que no tuvo

una dictadura que nunca fue derrotada sino que llegó a su fin con un pacto pragmático entre los actores políticos empujados eso sí

por las libertades en la calle que si bien permitió un nuevo régimen constitucional de mayores libertades supuso también

y sobre todo falta de voluntad para aplicar una memoria histórica democrática que permita de verdad cerrar las famosas heridas de las que tanto se habla

no ha sido posible cerrar las heridas producidas por la guerra y la dictadura entre otras cosas porque las leyes del nuevo sistema la monarquía parlamentaria del setenta y ocho

memoria justicia reparación y garantías de no repetición

son absolutamente necesarios para cerrar esas heridas de las que tanto se habla y que parece que molesta a algunos sectores herederos del franquismo en algunas ocasiones principios que están avalados por la comunidad internacional y que cuentan también con un amplio respaldo en nuestra sociedad

tanto en el ámbito competencial del estado como en el ámbito de nuestra comunidad autónoma no han sido suficientes porque a día de hoy seguimos sin contar con los instrumentos necesarios

memoria justicia reparación y garantías de no repetición por lo tanto nosotras creemos que es oportuno impulsar una ley integral de memoria histórica en euskadi

y que creemos que tienen clarísimo también las asociaciones que se dedican a la memoria histórica y por esa razón es por la que vamos a dar nuestro respaldo

esta proposición de ley que debería en nuestra opinión tener el respaldo de todos los grupos

para después mejorarla adecuarla entre todos y también contando con las asociaciones memorialistas y con diferentes profesionales la proposición de ley

sin lugar a dudas y estoy seguro que han hecho un excelente trabajo

seguro pero hoy no aprobamos o rechazamos el contenido de la ley sino que vamos a aprobar o rechazar tramitar la proposición de ley

en nuestra opinión es si creemos que es necesario impulsar una ley integral de memoria histórica o si creemos que no es necesario impulsar una ley de memoria histórica eso es lo que se debate hoy aquí en realidad si hoy votamos a favor

y como creemos que deberían hacer al menos partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi iniciaríamos un proceso de trabajo para elaborar una ley de memoria histórica de euskadi y lo podríamos hacer con la participación de los diferentes agentes de manera especial de las asociaciones memorialistas

con la participación de todos los grupos de esta cámara pues todos los grupos de esta cámara tenemos legitimidad para hacerlo si hoy votamos en contra en cambio perderemos una oportunidad para comenzar este trabajo y por lo tanto solo retrasaríamos algo que tarde o temprano haremos porque tarde o temprano este parlamento va a aprobar una ley integral de memoria histórica y eso es algo que lo saben ustedes perfectamente señoras y señores parlamentarios del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi cuanto antes comencemos no importa quién sea el que traiga la iniciativa al igual que cuando trajimos nuestra proposición de ley de reparación jurídica a las víctimas de la dictadura el gobierno vasco

eso sí esta vez han tenido que cambiar de argumentos porque los utilizados en la anterior ocasión quedaron totalmente desacreditados por inconsistentes

y sin impugnación alguna por parte de ningún actor político ni tribunal ninguno era un argumento sin sentido alguno un argumento

pero esta vez aunque el gobierno ha tenido que cambiar de argumentos tampoco ha presentado en nuestra opinión unos argumentos con mucho fundamento

esto a nuestro grupo nos hace reflexionar sobre cuáles son las razones reales por las que este gobierno rechaza de manera sistemática las iniciativas legislativas de la oposición de izquierdas en especial con una cuestión tan sensible como la memoria democrática de nuestro país una cuestión donde seguramente en el fondo de los contenidos

al menos entre partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi

por eso no lo entendemos muy bien el gobierno como ya se ha explicado utiliza dos argumentos en su criterio para rechazar esta proposición de ley el primero en nuestra opinión es absolutamente subjetivo al señalar que la proposición no toma en consideración las normas ya dictadas en esta materia en el parlamento vasco

aprobadas además de subsanable en el trámite de la ley no es sinónimo de no tomarlas en consideración a la hora de redactar la proposición por lo tanto estamos ante una mera escusa para justificar el rechazo del gobierno

supone en nuestra opinión un absoluto desprecio al papel que los grupos parlamentarios tenemos en cuanto a nuestra labor de impulso legislativo el gobierno considera que hay que encomendar al instituto de la memoria gogora la elaboración de un informe para determinar si es necesaria una ley de memoria o no bien

es una opinión respetable pero no es un argumento de peso para que el gobierno emita un criterio contrario a que este parlamento tramite una iniciativa legislativa traída por un grupo de esta cámara nosotros creemos sinceramente

ante una iniciativa sobre memoria histórica traída por un grupo de la oposición seguramente

del partido nacionalista vasco y del partido socialista su voto contrario porque es realmente difícil y lo saben para cualquier grupo mínimamente democrático votar en contra de una iniciativa legislativa destinada a que podamos desarrollar una ley de memoria histórica en un país como el nuestro

no estamos votando una ley estamos votando iniciar el trámite para elaborar una ley sobre la base de la proposición planteada y por eso

y yo se lo reprocho al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi

impidiendo la toma en consideración de una iniciativa que puede permitirnos a todos los grupos trabajar en la elaboración de una necesaria ley de memoria histórica que suscite

es la segunda vez en esta legislatura que partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi impiden la tramitación de una proposición de ley relacionada con la memoria histórica

siempre hay alguna excusa para rechazarlas supongo que queda muy feo rechazarlas porque sí

de la oposición en el programa legislativo se ha dicho también presentado por el gobierno para esta legislatura no hay ni rastro de la memoria histórica no está por lo tanto entre los planes del gobierno para

impulsar legislación en relación a la memoria histórica no pasa nada nosotros aunque lo lamentamos no lo vamos a criticar hoy porque el gobierno no es el único actor con capacidad para impulsar legislación y por lo tanto lo que queremos hacer hoy es poner en valor que tenemos

un parlamento vasco donde supuestamente reside la soberanía popular y donde hay grupos que tenemos capacidad para impulsar legislación en este caso sobre memoria histórica lo que sí nos parece impresentable no es que los partidos del gobierno no hayan planteado en el seno del mismo la necesidad de impulsar una ley de memoria histórica

ustedes rechacen su mera tramitación nos parece impresentable que hagan ustedes esto con un tema tan sensible como es una memoria democrática

brutal y terrorífica y que todavía no hemos hecho todas las cosas que tenemos que hacer creo que van a cometer hoy un nuevo error un segundo error como el que cometieron el día que defendí en esta tribuna nuestra proposición para la reparación jurídica de las víctimas de la dictadura

era el exceso competencial y la imposibilidad supuesta de que una ley autonómica pueda declarar la ilegitimidad e ilegalidad de las condenas y tribunales franquistas hoy en los argumentos remitidos por el gobierno no se dice nada de este asunto

también se incluye la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de esas condenas y tribunales golpistas espero que no sea que no se hayan tomado la molestia de no leerse

señoras y señores parlamentarios del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi en nuestra opinión en este país es oportuno y necesario elaborar una ley integral autonómica de memoria histórica democrática no se trata y desde luego nosotros no pretendemos con nuestro voto de hoy rechazar lo realizado hasta ahora en absoluto de hecho algo tenemos que ver en lo realizado hasta ahora también quienes como yo militamos en izquierda unida se trata

para la cuestión sobre la base de lo ya existente de lo ya realizado se trata de trabajar entre todos esa ley de memoria histórica

yo les pido que no vuelvan a cometer el error que ya cometieron rechazando la propuesta que yo traje a esta cámara hace unos meses algunos de ustedes reconocieron a posteriori que tal vez se habían equivocado con esa decisión les pido que se olviden de si la iniciativa la trae el grupo tal

y pongámonos todas y todos las pilas para que este pequeño país que tanto ha sufrido tenga una memoria democrática digna izan zirelako gara garelako izango dira esta es la frase que me enseño

es una frase muy importante que tenemos que llenar de contenido

la posibilidad de iniciar el trámite para dentro de un tiempo tener una ley de memoria histórica integral estoy convencido que tarde o temprano este parlamento va

yo les pido que no hagan tacticismos políticos

a favor y que trabajemos entre todas y todos para llegar al mayor acuerdo posible para una ley integral de memoria histórica eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

la verdad es que no es fácil todo lo contrario es difícil intervenir en el turno en contra

realizar la votación posterior en el mismo sentido con respecto a la toma en consideración porque hablamos de la toma en consideración de una ley sobre memoria histórica lo digo

creemos que es posible una ley vasca de memoria histórica de memoria democrática

y garantía de no repetición que honre a quienes se esforzaron por construir el régimen democrático de la segundo república quienes sufrieron la guerra civil

pero la razón del posicionamiento del grupo socialista en esta toma en consideración

precisamente la voluntad de que esa ley exista y que se haga desde el más amplio consenso y acuerdo de las fuerzas y tradiciones políticas vascas pero sobre todo que tal y como dice la propuesta la proposición de ley presentada y defendida hoy por el señor arzuaga sea vasca esto es que tenga en cuenta política realizada desde las instituciones vascas en la puesta en valor recuperación y reconocimiento de la memoria histórica y de las víctimas del franquismo en ese sentido debo decir y reconocer que las instituciones vascas no han permanecido impasibles

en relación a las políticas públicas de memoria histórica no han mirado como en otros lugares en españa hacia otro lado ante la magnitud de la represión llevada a cabo

han venido pronunciándose y desarrollando acciones decretos programas planes en el gobierno vasco en el parlamento vasco en las instituciones forales

siempre se han citado ya algunas de las actuaciones realizadas

hasta la ley del dos mil dieciséis pasando por la creación de gogora en el dos mil catorce y otras actuaciones en todas esas actuaciones de memoria pública democrática

en algunas como la ley de memoria del dos mil siete impulsada

en el decreto porque lo firmó idoia mendia entonces consejera de justicia

en uno y otro lado hemos apoyado esas políticas públicas de memoria lo hicimos en el dos mil catorce y lo hicimos en el dos mil dieciséis estando ya el lehendakari urkullu por eso

que el partido socialista sí tiene claro que es necesario una ley de memoria histórica vasca como lo hay razones también para que la haya en andalucía como hay razones para que la haya en valencia ya como hay razones para que la haya en cataluña ya

señor arzuaga con independencia del posicionamiento que mantenemos hoy en el pleno

no solo del de el análisis riguroso de las políticas públicas que hasta ahora se han realizado sino también

a las organizaciones sindicales sociales memorialistas que nos pueden hacer un trabajo impresionante para abordar de una manera mucho más participada esta propuesta conjunta de ley de memoria histórica integral vasca es por eso que es cierto que hemos presentado una

que atienda esas consideraciones que haya un informe de gogora ya se ha citado sobre esas políticas públicas llevadas a cabo desde los años ochenta por parte de las instituciones y mientras ese informe se realiza podemos empezar ese

y memorialistas pudiera pero no voy a entrar en los contenidos de su propuesta sabe usted que no estamos de acuerdo con la que realiza no la compartimos

parte de las disposiciones que figuran nosotros entendemos que exceden den ámbito competencial vasco y tendría vida si fuera aprobada así una vida bastante compleja en los tribunales por parte por la impugnación de las instituciones del estado pero

sí estamos de acuerdo porque están incluidas en la proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica presentada por el partido socialista hace escasamente dos meses

por tanto hablamos de la toma en consideración somos personas serias responsables políticos y estamos ante un tema que nos implica a todos y a todas estamos hablando de en este momento

el señor hernández como no lo estábamos a lo mejor tampoco antes cuando hablamos de la propuesta traída aquí

ante la necesidad de abordar un tema de país con el máximo consenso y apoyo

de poder encauzar esa propuesta de ley vasca de memoria que finalmente se consiga con independencia de que los avatares antes de la realización y la consecución de esa ley sean unos u otros yo también

histórica yo también lo comparto es cierto que en medio nos encontraremos con bastantes discusiones algunas insalvables y otras salvables pero estoy convencida de ello yo no creo que el gobierno vasco haya querido facilitar los acuerdos la votación o la posición del partido nacionalista vasco y el partido socialista

no creo que haya tenido esa intención porque las diferencias

de gobierno y se afrontan de una manera que el consenso refuercen las propuestas que presentamos pero no creo sinceramente que haya venido el gobierno

un posicionamiento diferente y hemos encontrado un modo de encauzar

en esa proposición no de ley no duden por tanto que nosotros cumpliremos el partido socialista cumplirá como cumplió muy tarde para las víctimas del franquismo en el dos mil siete como

ahora en el dos mil diecisiete presentando la reforma de esa ley como cumplimos con los decretos que se han mencionado en el país vasco como hemos cumplido en andalucía en baleares en cataluña en valencia como vamos a cumplir en extremadura y vamos a cumplir también

no solos acompañados de las asociaciones memorialistas que voy a estar de acuerdo con el señor hernández han mantenido la llama encendida por esas víctimas cuando

y la diligencia debida con todos ellos hemos cumplido en todos esos sitios que he dicho y por supuesto el país vasco en el que el compromiso de las socialistas con los derechos fundamentales y con su protección no lo vamos a hacer menos

cuando consigamos ese consenso no se construye democracia mientras tengamos cadáveres en fosas comunes en cementerios en cunetas y en lugares olvidados de españa no se construye democracia manteniendo enterradas sin nombre honra reconocimiento ni memoria a las víctimas no hay democracia sobre el silencio de las víctimas y sin su memoria siempre

por tanto acabaré invitando a todas las fuerzas políticas en el próximo debate que tendremos el jueves

no de ley que vamos a debatir a que nos acompañen a esa nueva memoria histórica que sea y se apoye

nuevo y en una verdad diferente un relato que se extienda a toda la sociedad con el objeto de que se abandonen los planteamientos tradicionales de todos fuimos culpables

revisionista sobre la necesidad de la equidistancia y la responsabilidad compartida nada o poco riguroso con la génesis y las causas de la guerra civil no queremos más memoria histórica sin memoria lo he dicho

se centre de una vez por todas en la destrucción y aniquilación por el franquismo de la democracia y de todas las demócratas queremos esa ley vasca

para que se aleje definitivamente la memoria de las teorías que identifican la

que esta fue producto de un golpe llevada a cabo por unos militares sublevados contra el gobierno legítimo y especialmente porque pasan página sobre el hecho indiscutible

liberal democrática y radical que se había encarnado en amplios sectores de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo diecinueve

este objetivo de aniquilación planificada fue el que acompañó al golpe

anclemos esa memoria histórica en un nuevo discurso que la envuelva de valores democráticos como todas las memorias de virtudes cívicas de derechos humanos de convivencia y de diálogo contribuyendo a la prevención de la violencia

y al fortalecimiento de la democracia muchas gracias eskerrik asko romero

hori bultzatu eta bateratzeko sortu genuen gogora institutua este país está comprometido con la recuperación de la memoria histórica y lo ha demostrado con hechos desde comienzos de la década de los ochenta y los noventa y con una actividad creciente hasta nuestro días

instrumento básico de pedagogía democrática y de garantía de no repetición y euskadi ha sido pionera y es referencia en la puesta en marcha de políticas públicas de memoria

justicia y reparación que tienen reconocidas todas las víctimas de violaciones de derechos humanos este parlamento ha sido pionero en la aprobación de iniciativas normativas para impulsar regular y dar coherencia a esas políticas públicas de memoria llevamos pues un largo camino recorrido llevamos pues mucho tiempo caminando

y también de analizar lo realizado y evaluar los instrumentos en marcha con el objetivo de dar un nuevo impulso a las políticas de memoria en euskadi

no persigue ese objetivo compartido y positivo

evaluarlo y seguir consensuando medidas constructivas de futuro no no es esa su intención la pretención de euskal herria bildu es otra

enfrentar desunir y rivalizar con otros grupos políticos especialmente con algunos en torno a la memoria histórica cuando lo que nos corresponde precisamente es

nuestro grupo está a favor de seguir trabajando por la memoria histórica con rigor y responsabilidad desde el consenso paso a paso con realismo garantizando pasos firmes y efectivos y no vamos a secundar escenificaciones interesadas y enfrentamiento

por eso y sin ninguna vergüenza vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley ustedes deben saber y reconocer que este parlamento ha trabajado mucho y durante mucho tiempo en esta materia y no es de recibo que pretendan ustedes ahora como si hasta ahora no hubiesemos hecho nada ustedes deben saber

deben saber que este parlamento ha realizado una gran labor contribución legislativa

una referencia por otra parte con bastantes nueces y menos ruido nuestro compromiso con la recuperación de la memoria y con los derechos de las víctimas es coherente consistente jurídicamente viable funcional maduro responsable y efectivo que son precisamente las carencias que vemos a este proyecto porque la iniciativa de euskal herria bildu es

euskal herria bildu ignora el marco normativo propio concretamente la ley cuatro barra dos mil doce de creación del instituto gogora esta ley es de facto ya la ley vasca de memoria histórica la proposición de euskal herria bildu es incoherente con este marco normativo que lo que necesita es verse reforzado y potenciado

la iniciativa es prescindible porque los contenidos de la proposición de euskal herria bildu pretenden regular líneas de actuación que ya están consolidadas hoy a través de gogora

porque de hecho estas actuaciones ya se están desarrollando de un modo viable y normalizado y usted las conoce nada menos que dieciséis de los artículos que sí hemos leído señor hernández dieciséis de los artículos propuestos pretenden legislar sobre actuaciones que están ya consolidadas y en marcha tres la propuesta es discriminatoria euskal herria bildu establece distinciones en el tratamiento de las víctimas asesinadas entre mil novecientos treinta y seis y mil novecientos cincuenta y nueve y las asesinadas

la diferencia indemnizatoria es muy relevante y no está justificada en el texto cuatro la propuesta es inviable jurídicamente

y es inviable jurídicamente eh bildu

y plantea duplicidades y discriminaciones entre víctimas y estas disfunciones abocan a la inviabilidad de la proposición tanto en el ámbito de la legalidad como en su gestión

en disfunciones y duplicidades paradójicamente parece como que euskal herria bildu pretende que suplantemos

porque depende de él y de su legislación la proposición es inmadura

la proposición de euskal herria bildu ignora la realidad ustedes se abstraen de la realidad y redactan un listado de deseos a la carta y algunos manifiestamente inviables

a actuación práctica alguna no es que vayamos busquemos una ley más o menos ambiciosa buscamos una ley viable que no suponga un brindis al sol

de que no se van a cumplir una actitud muy grave cuando hablamos de memoria histórica porque estamos hablando de víctimas entre quienes se crea unas falsas expectativas con el consecuente proceso de revictimización y por fin esta iniciativa

la intención última de euskal herria bildu es propagandística hasta la fecha las políticas de memoria y convivencia han sido siempre objeto de un especial esfuerzo de consenso y acuerdo entre los grupos políticos existe una ponencia específica precisamente con intención de preservar estos temas del rifirrafe partidario

hasta la fecha hemos avanzado con paso firme y sin fisuras con más consenso y menos propaganda

han dado a conocer su iniciativa en una rueda de prensa propaganda no la han compartido con ningún ninguno del resto de los grupos políticos propaganda no han dialogado con nadie en este parlamento y fuera de este parece ser

de su órbita porque con otras no propaganda no esperen por tanto que secundemos sus campañas de propaganda no estamos aquí para eso este parlamento tiene una larga trayectoria también en políticas de memoria gracias al trabajo de este parlamento nuestro país cuenta con un marco normativo que ha sido pionero y es una referencia reconocida

y pausada sobre el futuro de las políticas públicas de memoria y estamos dispuestos analizarlas con ustedes analizar las necesidades las potencialidades las carencias y los instrumentos con los que contamos estamos dispuestos abordar esta cuestión con rigor a realizar un diagnóstico serio debatir

incluidas las de carácter normativo o legislativo no se trata por tanto de rechazar la suya para traer otra nosotros se trata de dotarnos de un buen instrumento y además que sea fruto del consenso y del diálogo no estamos dispuestos a abordar esta materia tan relevante desde una sala de prensa con precipitación e improvisación con una actitud propagandística e interesada

prescindible discriminatoria jurídicamente inviable disfuncional inmadura e irresponsable en definitiva pura propaganda no estamos dispuestos secundar esta proposición de euskal herria bildu porque no cuenta con los mínimos exigibles a este foro legislativo

una ley integral de memoria histórica estamos votando si esta es la base para una ley integral de memoria histórica y nuestra respuesta es no

qué es aliviar las responsabilidades del estado qué es una declaración de intenciones qué es irresponsable

por qué no lo ha hecho el gobierno vasco cierto bi mila zortzian

aquí el tema y yo creo que voy a dar en el clavo es que el pnv entiende que hacer algo que en su momento no le viene bien

le incomoda es el objetivo de eh bildu

hacemos algunas cosas precisamente con la voluntad de molestarles pero no es esa nuestra causa la causa nuestra no es molestar al pnv con nuestras iniciativas nuestra causa en este caso en concreto es buscar el reconocimiento y la reparación de las víctimas y en todo caso si alguien se tendría que sentir agraviado tendríamos que ser nosotros

sin argumentos se nos está echando para atrás una iniciativa que yo creo que es necesaria

ya ha hecho un informe sobre las vulneraciones de derechos humanos durante la guerra civil y en dos años en febrero de dos mil dieciséis

culminándose porque tenía dos años de plazo para ser presentado

porque he visto además borradores y sobre la cual se basa también esta ley conocemos la casuística conocemos las iniciativas los planes los proyectos y ahora les dotamos de garantía jurídica hablan ustedes de la posibilidad de traer una ley

pero me da la sensación de que es una actitud absolutamente y peligrosa tramposa porque nos obliga a dar el debate sobre unas nuevas bases que van a ser más proclives a su posición y que yo sí que tengo la sensación de que

a la baja y es peligrosa porque pone en tela de juicio la capacidad que tenemos como grupos parlamentarios de traer iniciativas legislativas a esta cámara bajo esa acusación de que lo utilizamos para hacer propaganda la conclusión que saco de todo esto es que nuevamente

va a ser una noticia inmejorable para el partido popular y por otro lado por otro lado es una bofetada tal vez en la cara de eh bildu a todas las victimas que tenían un expectativa que con esta o con otra ley

reconocidos y reparados todos sus derechos eh bilduk ez du amaitu mesedez

no estábamos juzgando ni criticando ni valorando

hasta ahora por los diferentes gobiernos vascos y creo que eso ha quedado claro en las

esta proposición de ley y creo que ha quedado claro también que en la misma se recoge se tiene en cuenta lo realizado hasta el momento desde luego

en una ley de memoria histórica integral que no tuviese en cuenta lo que se ha realizado hasta el momento entre otras cosas porque como ya he dicho antes también

que también ha estado en este parlamento y en gobiernos vascos anteriores haciendo acciones

en esta materia pero nosotros sí que creemos señor iturrate

y si no es así y si usted sostiene que no es así entonces es que estamos de acuerdo todos

en que necesitamos que euskadi necesita una ley integral de memoria histórica esto es así yo pregunto esto es así

el contenido de la proposición de ley desde luego ya lo he dicho antes seguro que es mejorable y seguro que hay cosas en las que no estamos de acuerdo pero nosotros lo que queríamos hoy poner en valor una oportunidad para iniciar el camino puesto que en el programa de gobierno no se dice nada de presentar una iniciativa legislativa

de manera muy legítima no lo incluye entre sus programas de gobierno los grupos parlamentarios de la oposición grupos democráticos que están en esta cámara porque les ha

tienen derecho de presentar iniciativas legislativas y yo no sé si hay elementos de propaganda

seguro que hay elementos de propaganda cada vez que cualquier grupo trae una iniciativa a esta cámara claro que sí y a mí además me parece absolutamente legítimo porque la propaganda

de las iniciativas que los grupos y partidos defienden y presentan yo no lo veo como algo negativo me parece algo positivo porque propaganda hacemos todos

yo he visto demasiadas veces en el teleberri las fotos de la propaganda utilizando la memoria histórica y es verdad que en los últimos tiempos hay un cambio

no me parece argumento para echar para atrás una proposición de ley que nos podría posibilitar como decía llegar a acuerdos amplios para tener una ley integral de memoria

nuestro grupo va a votar a favor de la misma yo no voy a entrar al contenido de esa proposición de ley porque efectivamente hay cosas que cambiaría hay que cosas que introduciría etcétera y las cuestiones

legal al igual que en el anterior debate que tuvimos también cuando trajimos nosotros la de reparación jurídica son cuestiones que también se pueden limar

y además hay cuestiones en las que si nosotros tenemos la voluntad de llevarlas adelante en una ley que sean otros los que vengan y saquen la tijera si nosotros creemos que una cuestión es justa y debe estar incluida en una ley creo también que hay que defenderlo es también parte del sistema democrático

y si el judicial considera que no se ajustan a lo que se puede hacer pues ya nos lo dirá pero no nos autocensuremos nosotras y nosotros mismos

sí gracias señora presidenta vamos por partes para aclarar cuál es la posición del partido socialista porque efectivamente

yo le voy a decir al señor hernández cuál es la apuesta del partido socialista en esta materia sin perjuicio

una ley de memoria vasca tengamos nosotros también que ceder en determinados aspectos para conseguir esa ley vasca integral de memoria esa es la posición del secretario bueno fernando martínez secretario de memoria histórica de la comisión ejecutiva federal del psoe que establece el compromiso del partido socialista con la reforma de la ley de memoria estatal el desarrollo y aprobación de leyes autonómicas de memoria histórica aquí está esta es la postura del partido socialista obrero español y del partido socialista en euskadi y por tanto esa postura asumida por el secretario general pedro sánchez es la que yo voy a intentar

no me importa tanto el cómo si consigo el qué si consigo esa ley de memoria y por tanto considero que para que salga tenemos que estar de acuerdo también en el cómo todas las tradiciones políticas de este país yo sé lo que usted ha trabajado y su partido y muchos de los que estamos aquí en esta materia y sé quién no ha trabajo

pero la voluntad del partido socialista quiero dejarla clara insisto esto es una toma en consideración no voy a hablar del contenido de la propuesta de eh bildu lo he dicho antes

mi propuesta la propuesta del partido socialista que obviamente tendrá que ser consensuada y debatida

las fuerzas políticas de esta cámara se parecen mucho a la que hemos aprobado con podemos

esa es la propuesta que nosotros queremos avanzar y defender sobre la base de lo actuado ya y de lo trabajado que es mucho las instituciones vascas

si hay esa voluntad política del qué en vez del cómo o de priorizar el qué por encima del cómo aunque también importe espero encontrarnos proposición no de ley y si no nos encontramos pues el partido socialista seguirá insistiendo dentro del gobierno vasco para que se haga ese informe de gogora se apruebo o no y para que nos pongamos a escuchar a las asociaciones

esa ley vasca integral de memoria histórica que para nosotros y para nosotras

necesaria y acertada no con los contenidos que no debatimos hoy de la propuesta de eh bildu sino con los contenidos que todas pactemos porque el único camino más valido y más eficaz para las víctimas también las del franquismo

con el mayor consenso y con el camino más fácil

reitero esta es una cuestión también de país como son las que debatimos en la ponencia de memoria son cosas distintas la memoria histórica y lo que estamos trabajando

con más discreción que propaganda a veces no siempre en la ponencia

las compartimos por eso yo he priorizado el qué espero encontrar

qué la próxima semana y desde luego una vez se haga el
informe de gogora dentro de ocho meses muchas gracias eskerrik asko romero anderea iturrate jauna euzko abertzaleak zurea da hitza

insistía en su temor en que podamos traer una propuesta a la baja una proposición de ley a la baja y que no estarían dispuestos o que no quieren pasar por ahí lo que no estamos dispuestos nosotros es a hacer

una ley que esté creando falsas expectativas a las víctimas y que vaya a

no regula absolutamente nada es una mera declaración

que no tenemos competencia para poder proporcionar el artículo treinta y uno la declaración de nulidad de las sentencias franquistas lo dijimos en el debate anterior y lo repetimos no somos competentes y además hay una iniciativa legislativa en el congreso de los diputados y lo saben y sin embargo ustedes lo incluyen

haciendo una llamada al gobierno del estado a que presente un recurso al tribunal constitucional porque ustedes

artículo veintiuno el derecho de restitución mero carácter declarativo sin establecer ámbitos procedimientos ni ejercicio al derecho a partir del capítulo quinto un catálogo

el titular actual de los bienes confiscados devolverá los bienes confiscados al titular original y cómo con qué capacidad coercitiva con qué capacidad de imposición artículo treinta y nueve simbología retirada lo antes posible qué es lo antes posible en el ámbito jurídico qué seguridad es esa lo antes posible dice la ley artículo cuarenta y cuatro garantía de no repetición prevé que se dicten medidas legislativas y administrativas en el parlamento vasco que impidan entre otros las detenciones incomunicadas

primero creando falsas expectativas y segundo llamando al estado que no quiere

a que además vuelva a intentar impedir que otros lo hagan de una manera factible de una manera viable

a las víctimas señor arzuaga en la cara de no sé quién pero es dar una bofetada no podemos modificar ni la ley de amnistía ni la de enjuiciamiento criminal ni el código penal

a nosotros no nos incomoda debatir sobre memoria histórica nos incomoda debatir

que es una mala proposición que se presenta mal presentada y que se presenta sin consultar con ningún grupo parlamentario

ala propaganda hutsa egitea la ley

más de seis meses antes de que el gobierno vasco presentase

el primer borrador y durante esos más de seis meses se habló con ustedes

en más ocasiones ustedes conocían el borrador pudieron hacer alegaciones cuando el gobierno presenta un proyecto de ley lo conocen las asociaciones

hay un proceso de reclamaciones hay un debate no aquí no hay nada aquí hay una trágala y es por la trágala por donde no estamos dispuestos a pasar

es que es tan evidente que no han querido ni debatir que se debatiese conjuntamente la proposición de ley de hoy y la proposición no de ley de la semana que viene porque no les interesa llegar a un acuerdo en este tema probablemente luego llegaremos

pero en esta ocasión ustedes no han querido llegar a un acuerdo ustedes han querido hacer un acto de propaganda y me parece muy bien es muy legítimo es muy legítima la propaganda pero cada uno

y no hacemos a pachas nosotros no estamos aquí para pagar las campañas de propaganda de euskal herria bildu o de la izquierda abertzale no estamos para eso y por eso vamos a votar en contra

muy conscientes y sabiendo lo que hacemos y por no defraudar expectativas de las víctimas del franquismo y porque estamos comprometidos con la verdadera memoria histórica en este país besterik ez eskerrik asko

buenos días gracias presidenta señoras y señores consejeros

esta toma en consideración y las votaciones tenemos que decir que mi grupo siempre estará abierto al reconocimiento

al resarcimiento de los perjudicados pero siempre con soluciones posibles con soluciones factibles por eso hemos votado en contra de la toma en consideración de la proposición no de ley

por tres razones la primera de ellas por su falta de acomodo a la legalidad constitucional estaríamos dando entrada

sometido a serias contradicciones con el ordenamiento jurídico innegables

iba a ser impugnado ante el tribunal constitucional y ello con la sola lectura de la exposición de motivos más allá las dificultades son aún mayores y se acentúan

entendemos que iniciativas de estas características deben de ser en la medida que no la hayan sido reguladas estudiadas además

y con acomodo a la legalidad constitucional o en su caso además con la derogación en esa misma cámara de legislación anterior o

o códigos de leyes orgánicas en vigor eso es un hecho de primero

de parlamento es decir es que es así hay cosas que no se pueden hacer y no se pueden hacer aquí

por eso mismo algunas consideraciones hechas por algún otro portavoz eran muy adecuadas y entendibles seguimos observando los mismos

vulneración de la ley de amnistía del setenta y siete habilitación además a organismos administrativos para construir verdades judiciales verdades penales y en definitiva

de seguir buscando fracturas sociales con apariencia de legalidad

imposible que se apruebe una iniciativa de estas características en un parlamento autonómico sobre las bases planteadas en la propia iniciativa es imposible la segunda razón es que estamos de acuerdo con el criterio

básicamente en su primer párrafo que dice manifestar su criterio desfavorable a la toma en consideración de la citada proposición de ley

y yo creo que ha quedado también muy claro si un gobierno tiene que implementar medidas normativas y que haya hecho un análisis superficial de la iniciativa ha considerado no procedente la toma en consideración además por diversas dificultades que entraña ahí se han manifestado algunas estoy seguro que las más graves

está claro que aumenta exponencialmente las dificultades para un estudio de esta iniciativa con solvencia jurídica además el hecho de poder estudiar normativamente y eso se dice en el criterio

lagunas que eventualmente puedan constatarse y eso puede ser así no implica la adopción de medidas integrales

ya se han regulado además y otras son de imposible encaje jurídico constitucional y otras son

o en favor de la discrecionalidad política basada además en la inseguridad jurídica está claro que muchas personas vascas de ambos lados de la contienda y muchas otras

y privaciones de sus derechos la sociedad española y la vasca

para la recuperación de la memoria y por la reparación de los perjudicados ese esfuerzo está hecho en su mayor medida y es posible

de gestión administrativa que hoy se hace puede tener efectos de partida

de llegada y la tercera razón es que quien aun se mueve en la dependencia política con organizaciones violentas no puede presentarse hoy

entre este momento del análisis de esta iniciativa y los momentos históricos analizados la iniciativa como si nada hubiese pasado señorías esta iniciativa sin encaje jurídico constitucional posible no buscaba la convivencia

acabo esta iniciativa no comparto la afirmación del señor iturrate no es inmadura lo que es

esta propuesta de abrir una comisión de investigación no necesita en realidad más apoyo

la presentación en la comisión de educación del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete de la nueva presidenta de la autoridad vasca de la competencia doña alba urresola fue una comparecencia verdaderamente

esclarecedora nos comunicó y permítanme que haga un breve repaso nos

a la autoridad vasca de la competencia se abrió un expediente de investigación sobre cómo había transcurrido este servicio entre el año dos mil tres y el año dos mil quince el principio de este servicio

y de lo que luego fue la causa de su mal funcionamiento fue que en el año dos mil tres se abre una licitación

a siete empresas y no vuelve a haber una licitación

por lo tanto tenemos una situación desde dos mil tres en las que solo siete empresas están homologadas para prestar este servicio

es una limitación de la competencia y por tanto una limitación a conseguir el mejor servicio posible que es claro y obvio

en los que solo siete empresas están homologadas para prestar ese servicio y el sistema era claro y era transparente y cualquier persona sobre todo dentro del departamento

había nueve lotes de adjudicación y solo siete empresas homologadas

en el segundo año de los cuales se volvía a repetir una oferta económica bueno pues cada empresa elegía el lote

que deseaba para sí y ofrecía un precio muy razonable y en el resto de lotes ofrecía el precio máximo posible sabiendo así que no los conseguiría entonces cada uno elegía su lote

y en ese lote ofrecía un precio razonable y en los demás el máximo pero aunque se dividía

se hacía la licitación cada tres años el segundo año se tenía que volver a presentar un precio pues en el segundo año ya el descaro era total cada empresa solo presentaba un precio por lote al que estaba atendiendo y no por los otros

con esto quiero decir que tal como nos explicó la presidenta de la autoridad vasca era claro nítido y obvio la concertación

en dos mil quince falla la autoridad vasca de la competencia

falla y califica la actuación como muy grave todos sabemos que normalmente las faltas se califican como leves graves o muy graves la autoridad vasca de la competencia califica esta actuación como muy grave e impone una multa de dieciocho millónes de euros

y no solamente eso sino que además cifra el perjuicio para la administración en siete millónes largos anuales hay veces que hablamos de ochenta y uno millónes porque cogemos esa cifra

por los años investigados esto no es justo esto es otra cosa que habrá que

porque cada año fue diferente incluso algunos años podía haber sido superior sobre todo en las épocas de bonanza y vamos a quedarnos con la cifra oficial

la administración sufrió un perjuicio de más de siete millónes de euros siendo esto ya digno de que se mire y se investigue por qué ha pasado eso en sí mismo ya es digno las cosas se agravan cuando las empresas recurren ante el tribunal superior de justicia del país vasco

y el tribunal superior de justicia del país vasco falla si no me equivoco el año tengo aquí la en junio

de dos mil diecisiete en junio de dos mil diecisiete apenas el año pasado falla que

son acertadas las convalida pero disminuye la

al gobierno vasco corresponsable en ese perjuicio a la administración entonces ya es cuando uno se queda con la cara a cuadros dice hay

del tribunal superior de justicia del país vasco que declara que el gobierno vasco es corresponsable

que se evalúa el último año siete millónes largos de euros que puede estar en el periodo total entre sesenta y ochenta millónes de euros y no pasa nada y no pasa nada yo la verdad quizá ingenuamente cuando vino

y no se ha abierto una investigación interna en el departamento y nos contesta que yo sepa no a ver

no es digno de investigarse qué ha pasado qué decisiones erróneas se han tomado por qué se han tomado así

por ignorancia o también no hay que descartarlo por lucro se ha permitido que un sistema que en su concertación

no se ocultaba y que ha supuesto solo para la administración un daño que

ha sido de siete millónes el último año algo más y entre sesenta y ochenta millónes de euros a lo largo de todo el periodo de dos mil tres a dos mil quince

de doce años y teniendo

no se investiga hay que investigarlo hay que saber qué ha pasado

y lo siento mucho esto es duro y es difícil pero hay que establecer responsabilidades responsabilidades que nosotros no vamos a hacer

no sabemos por qué han sido pero sean por dejadez sean por ignorancia o sean por lucro habrá que conocerlo y hay otro aspecto

pero es que tenemos que tener en cuenta que el servicio de comedor

el gobierno vasco abona el sesenta y cinco por ciento y las familias

y si el perjuicio en el último año para la administración fue de siete millónes pues para las familias debió rondar los cuatro millónes

o no el treinta y cinco por ciento lo pagaron las familias es otra cosa que tenemos que aclarar si cuando nosotros

nos referimos solamente al perjuicio de la administración o también estamos incluyendo

el daño económico que han sufrido las familias y eso durante doce años no nos queda más remedio que abordarlo

ha presentado esta iniciativa para abrir una comisión de investigación sobre el tema
muchas gracias eskerrik asko bengoechea anderea

hasta demostrar que estas siete empresas de catering uno pactaron al alza los precios de los menús escolares dos este pacto provocó un sobrecoste anual de al menos siete millónes de euros al gobierno vasco

no solo impide la autonomía organizativa de los centros no solo va en detrimento de la calidad de los menús no solo perjudica a la economía local sino que además

entre dos mil tres y dos mil quince pudo provocar un quebranto patrimonial de hasta ochenta y cuatro millónes de euros a las arcas públicas digo de hasta porque como ha dicho

pero además pudo provocar un sobrecoste a las familias de cuarenta y cinco millónes de euros en estos doce años si sumamos

hasta ciento treinta millónes de euros que están perdidos y a cambio tuvieron una multa de solo dieciocho millónes de euros

en dos mil diecisiete el tribunal superior de justicia del país vasco sentenció uno

existió dos que el quebranto económico se produjo y tres y lo más grave que el proceder contó con la pasividad del departamento de educación

leo expresamente que el gobierno vasco con su actuación

que actuaban de una manera asumible de cara al interés público sin que desde el gobierno vasco conste ni reacción

ni consulta ni prevención ni denuncia en contra qué ha pasado aquí pues hay que investigarlo investigar

ere bai y me detendré un momento en la cuestión del año patrimonial en dos mil dieciséis en marzo de dos mil dieciséis este parlamento este pleno el pleno de este parlamento aprobó una moción

uno decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que estudie si se ha producido un daño patrimonial la respuesta un año después

a esta demanda del parlamento realizada a petición del grupo eh bildu no deja lugar a la duda respecto al compromiso del gobierno en esta cuestión y dice el gobierno respecto al compromiso

circunstancia que no ha concurrido en este caso dada la inexistencia de reclamaciones presentadas toma ya

como no ha reclamado el siguiente perjudicado son las familias tampoco han reclamado por qué no han reclamado las familias para que se pueda reclamar un daño patrimonial dice la ley

esto se ha comprobado evaluable económicamente e individualizado

tenga el deber jurídico de soportarlo daño efectivo comprobado

económicamente y daño individualizado eso es lo que no se ha investigado hasta ahora cuánto ha sido el daño para que las familias y quienes se sientan

consideramos desde nuestro grupo que es misión del parlamento y que será misión de la comisión de investigación por un lado lógicamente determinar las responsabilidades políticas y administrativas

pero también como ha dicho la señora bengoechea conocer de modo fehaciente el daño patrimonial millónario que se ha producido porque más allá de los fríos números de los fríos

miles de personas miles de familias que han sufrido que han padecido esta situación injusta familias de la escuela pública vasca la más humilde y la más olvidada

no por gusto sino porque tienen que ir a trabajar familias con dificultades para llegar a fin de mes y familias que en muchas ocasiones necesitan recurrir a las becas de comedor en la confianza y que familias que pagan sus impuestos en la confianza de que esos impuestos serán destinados por la administración a un fin

les debemos esta comisión de investigación que ahora reclamamos zazpi enpresa

y eso exactamente es lo que nos trae hoy aquí garantizar esa transparencia no solo vale con hablar sino que hay que demostrarlo

y en este caso tampoco queremos que se nos olvide eso sería una falta de responsabilidad que como políticos o políticas nos toca

tenemos la obligación de aclarar de una vez por todas esta situación más que preocupante que se ha dado durante los últimos años de la gestión de los comedores escolares y desde luego hay que garantizar

como poco hoy tenemos la responsabilidad de dar respuesta a la sociedad pero una respuesta también a las familias

directa de los comedores que sigue manteniendo el departamento de educación y este gobierno no es nuestro objetivo buscar responsabilidades penales porque no es nuestro trabajo y para eso no estamos aquí

el procedimiento administrativo está abierto y tampoco nos corresponde meternos ahí pero la búsqueda de responsabilidad política sí que es nuestra obligación esa responsabilidad política que puede permitir

para revisarlo y para intentar dar una respuesta que nos piden todos los agentes que rodean al tema de los comedores

en esta cámara el tres de marzo del dos mil dieciséis en relación a estos comedores esto es presente y esperamos que sirva para el futuro pero no olvidemos que el pasado también lo tenemos que valorar y es lo que nos puede ayudar a no repetirlo eh bildu quiere y exige un modelo de comedores unido a las personas al servicio de las familias de las trabajadoras

que sea un comedor pero que no sea un comedero un espacio educativo más un lugar que sirva de nexo entre los productos entre los niños las niñas un espacio de desarrollo social y cómo no un espacio económico en su entorno incluso lo que hay hoy no se parece en nada a eso

sobre el reparto de los contratos de estos comedores un reparto que salta a las portadas de los periódicos y de la prensa en febrero del dos mil dieciséis

a esas siete empresas que ha quedado demostrado que sí se repartían el mercado que jugaban y pactaban con los precios y que resultaban adjudicatarias

esta sentencia después recurrida por las propias empresas efectivamente hace saltar a la luz pública los defectos de esta gestión mal llamada directa de los comedores implantada en el año dos mil

gestión directa pensada a la carta pensada a la carta para dar un servicio centralizado por una parte con pocas empresas beneficiadas un servicio unificado en todos los comedores de la comunidad autónoma vasca

una sentencia que complica más si cabe la situación del gobierno en este momento por la falta de reacción nada más pero una falta de reacción con esa incertidumbre que rodea el tema de los comedores una sentencia además que hace saltar por los aires la confianza de las familias que tienen en esta gestión en definitiva una gestión que ha demostrado ser fallida una gestión que ata de pies y manos a las familias

y cómo quieren gestionar los comedores laburbilduz hutsean geratu den kudeaketa zuzena familia guztiz lotzen

este mal llamado modelo de gestión directa genera dudas no da respuesta a las familias y solamente tiene una finalidad

que se reparten a diario en las escuelas públicas de la comunidad autónoma del país vasco

para volver a poner encima de la mesa si hay responsabilidad es nuestra obligación para conocer en qué medidas se han tomado medidas

y para valorar si este modelo de comedores escolares es el mejor y si es el que de verdad se demanda por quién por quien lo paga ni más ni menos

no a las personas que lo usan ni los que comen todos los días allá ni a las familias que lo asumen

un ejemplo claro todas las iniciativas que durante seis años eh bildu ha puesto encima de la mesa

la comparecencia en la comisión de educación de todas las empresas involucradas en esta trama se le puede decir para que dieran explicaciones el veinte de septiembre del dos mil diecisiete empiezan a llegar las respuestas

y curiosamente rechazando una detrás de otra desde ausolan hasta eurest

y tan sencillo como han decidido respetuosamente declinar la solicitud de comparecencia no me negaran que como poco sospechosos que todos respondan los mismo que todos se nieguen a venir a comparecer a la comisión de educación y que todos lo hagan a la vez hoy eh bildu

que no propaganda porque no vamos a usar esto de forma partidista ni electoralista porque no porque nunca lo hemos hecho además no nos vengan dirigiendo el debate por otros derroteros que no vamos a ir por ahí

vamos a ir buscando explicaciones y además porque no nos hace falta hacer propaganda presentamos una enmienda de adición

un único objetivo hacer la foto actual de estas semanas qué es lo que tenemos se están adjudicando no se están adjudicando necesitamos los datos una enmienda que solo dice que en tres meses necesitamos un arranque de esa comisión de investigación en la que desde luego estamos de acuerdo pero una foto actualizada en estos mismos días son datos son datos sencillos que se pueden encontrar

y se buscaran responsabilidades porque si hay responsabilidades se tienen que depurar no tenemos más remedio se deben tomar medidas y el departamento de educación tiene que actuar es nuestra obligación es más

demostraría que hay disposición por parte del departamento cosa que ahora tenemos dudas que están dispuestos a colaborar

tema de los comedores tengan que decir entendemos que es un beneficio para todos y para todas

por nuestra parte la postura absolutamente está clara eh bildu lo ha defendido durante unos cuantos años atrás y hoy vuelve a defender lo mismo

por el bien de las familias de las trabajadoras de los niños de las niñas y por el bien lo acabo de decir del mismo departamento gure aldetik jarrera argi dago legez besteko proposamenaren

pnl presentado por el grupo popular y por elkarrekin podemos

con las responsabilidades políticas relativas al proceso de adjudicación de la prestación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del gobierno vasco desde el año dos mil tres ya lo habíamos debatido la legislatura anterior una proposición no de ley muy similar

aquella vez presentada por el pp y el grupo mixto upyd y el debate que tuvimos fue relativo a la constitución también de una comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación

que todos conocemos en este caso lo único que varía es el objeto de la comisión de investigación comparándolo con el debate de la legislatura anterior pero con el mismo fin al fin y al cabo la construcción de una comisión de investigación en relación con la prestación de estos servicios de comedor ya en el dos mil catorce

pero ha sido un procedimiento que viene desde años atrás y que finalmente se cerró en febrero del dos mil dieciséis este expediente se inició

el pasado diez de octubre por una denuncia de una empresa en ese momento la investigación se centró en las licitaciones para contratar el servicio de los comedores escolares de gestión directa dependientes del departamento de educación la investigación se realizó desde el año dos mil tres hasta el año dos mil catorce centrándose en siete empresas principalmente concluyendo con una resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis y en dicha resolución

de reparto de mercado por ciertas empresas las mismas que han sido investigadas las sanciones se imponen en base a la ley de defensa de la competencia como infracciones muy graves

son recurridas ante la sala de lo contencioso del tribunal superior de justicia del país vasco

sentencias de junio del dos mil diecisiete en las que ratifica la resolución que ya adoptó la autoridad vasca de la competencia en la que manifiesta una práctica concertada de reparto de mercado

el comportamiento infractor de estas empresas una vez puestos en antecedentes y concluidas las impugnaciones por parte del tribunal superior de justicia el departamento de educación tenía que sacar de nuevo nuevas licitaciones para darle continuidad a ese servicio ese será la conclusión de todo este proceso

diseña unos nuevos pliegos encaminados a favorecer la competencia a eliminar las barreras de entrada se blindan los pliegos ante una posible concertación de empresas para corregir esa situación que daba lugar a un encarecimiento artificial de los precios definitivos que se establecían se ha demostrado que con los cambios que se introdujeron

que ha habido una pérdida importante de dinero y que si esta situación cambio a partir del dos mil quince en años anteriores es verdad que se podía haber hecho algo parecido

de empresas generando el reparto del mercado es totalmente contraria a esta situación porque como se ha demostrado estas empresas incurrieron en estas prácticas bien tras la resolución de la autoridad vasca de la competencia así como la ratificación de esos hechos por parte

mi grupo siempre ha sido favorable a la creación de las comisiones de investigación siempre que ha habido motivos claros

es verdad que en este caso se han demostrado prácticas contra la competencia empresarial y es por ello que no vamos a negarnos a la creación de dicha comisión pero si bien es cierto

pensamos sinceramente que no va a obtener conclusiones muy distintas a las que ya se adoptaron en la legislatura anterior

y depurar cuantas responsabilidades corresponden en el ámbito de la investigación parlamentaria y esta responsabilidad o competencia pensamos que no es nuestra sino de la autoridad vasca de la competencia

y quien ya ha sancionado a las empresas que han incurrido contra la competencia empresarial como ya he citado anteriormente

de la autoridad vasca de la competencia y dicha presidenta en ningún caso cito que hubiera habido ni complicidad ni favorecimiento por parte de la administración educativa

por tanto si esta administración con los medios con los que cuenta y el tiempo que ha dedicado a este caso investigando a las empresas durante tantos años

no ha llegado a apuntar ningún tipo de irregularidad en el departamento de educación no consideramos que nosotros vayamos a poder ir más allá ante un tema tan sensible como este la alimentación de nuestros hijos e hijas pertenecientes a centro públicos

que no podemos quedarnos inmóviles la resolución de la autoridad vasca de la competencia como la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco hicieron realidad tal situación

con los que hemos podido ver que las actuales normas de contratación pública son cada vez más garantistas de la competencia y de la libre concurrencia

para que estos casos no se vuelvan a dar para que no se generen acuerdos para sacar ventaja

en una enmienda firmada por el grupo nacionalista vasco y por el grupo de euskal herria bildu instábamos a que fuera el gobierno vasco quien pusiera en conocimiento de la fiscalía esta situación con el fin de que valorase si se podían derivar responsabilidades penales a que estudiara si se había producido un daño patrimonial

cuantas acciones legales fueran necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados y finalmente instábamos al gobierno vasco

analizasen y decidieran los pasos a dar con el objetivo de adecuar el modelo de gestión de los comedores de modo que en su caso cada centro público pudiese elegir libremente la forma de gestionar su comedor probablemente fue la novedad más importante de ese acuerdo

porque como he citado firmaron con nosotros la enmienda y llegamos a este acuerdo

consideramos que la autoridad vasca de la competencia junto con la fiscalía

la competencia y quien debe actuar en consecuencia en cualquier caso como ya he dicho al principio

como es costumbre en el grupo socialista no obstaculizaremos la puesta en marcha de esta comisión de investigación

ulertzen dut zuen obsesio bihurtu gara decía que los proponentes no quieren una comisión de investigación

o más herramientas para ese menester que la propia autoridad vasca de la competencia o la fiscalía u otros estamentos judiciales

pero no lo pueden decir ahora bien tengo que reconocer la habilidad del partido popular en torno a una cuestión la de convertir sus problemas que seguramente son insoportables para alguna parte de la militancia

de todos los que nos dedicamos a la vida pública en extender la mancha a todos para que sus pecados parezcan menores o parezcan excusables y en este viaje colectivo a los infiernos se encuentran unos aliados elkarrekin podemos

que diría rajoy se suma a este rito purificador pero se equivocan están ustedes equivocándose de plano en las coordenadas

esta iniciativa y las que se han sustanciando anteriormente traen causa

la avc pues bien en la comparecencia que lo ha mencionado antes la señora bengoechea y se ha mencionado aquí profusamente

sustanció el pasado mes de octubre la presidente de la avc dijo lo siguiente

durante el periodo en cuestión las mencionadas siete empresas licitaron el servicio bajo una apariencia de plena normalidad y plena competencia aunque no obstante desplegaron un patrón de conducta que provocó

eso es lo que pasó y eso es a lo que parece que hacen oídos sordos señores de elkarrekin podemos

señora bengoechea como ya he mencionado en alguna otra intervención hablemos con propiedad

y denunciando se llaman prácticas colusorias son pactos entre empresas para disminuir o eliminar la competencia entre ellas y por mucho que se empeñen se están empeñando reiteradamente

estas prácticas colusorias no tienen que ver exactamente con el mundo educativo sino que pueden darse otro orden del tráfico mercantil y en la vida económica estoy acostumbrándome a la desafortunada teatralización de la vida

y lo que supone esta cámara como caja de resonancia pero este empeño en unir las palabras fraude y departamento de educación o gobierno vasco es inadmisible inadmisible señores en primer lugar porque como decía la presidenta de la autoridad vasca de la competencia en su comparecencia y es literal

puesto que hay un archivo por parte de la fiscalía hay una sanción administrativa que está recurrida en los tribunales veremos de momento se han pronunciado en favor y ratificando la postura de la autoridad vasca de la competencia

por otro lado hay un auto de la fiscalía que residencia en las empresas la responsabilidad exclusiva en todo este lamentable proceder y dicta y esto es importante resaltarlo que ha habido un perjuicio a la propia administración en toda

se obvia un dato muy significativo a mi parecer muy significativo la autoridad vasca de la competencia

es administración pública es más es un órgano autónomo adscrito al departamento de hacienda y economía

se acusa al gobierno de una negligencia invigilando para evitar la concertación cuando al instante mediante el órgano competente habilitado establecido al efecto difícilmente un departamento del gobierno vasco puede ser

cuando hay otras instancias gubernamentales que han puesto de manifiesto la concertación las prácticas colusorias decía la señora

pues no deben ser tan obvias y evidentes como se quieren hacer ver aquí señora bengoechea y la prueba de ello es que se han tenido que tirar de indicios y presunciones para poder armar el caso leyendo la justificación de su pnl de su proposición no de ley

ni se insta realmente a nada sino que ya está todo prejuzgado ya está todo prejuzgado y bien juzgado el escrito es en realidad

es un camino además más efectista que efectivo nuestra enmienda recorre el camino opuesto y quiere poner en valor aquello que se aprobó aquí en marzo del dos mil dieciséis en especial

precisamente para soslayar la comisión de investigación porque se entendía y se entiende como una vía mucho más garantista la de la fiscalía una vía mucho más garantista para todos o no

por otro lado se veía necesaria la conveniencia de introducir en las condiciones de los contratos cláusulas destinadas específicamente a garantizar la competencia entre las empresas concurrentes

autoridad vasca de la competencia el gobierno lo ha hecho y lo sigue haciendo por lo demás la fiscalía ya se pronunció y dejó claro su dictamen con respecto a esa primera denuncia y no creo que nadie pueda decir que es un órgano al dictado del gobierno vasco

prueba de que los procedimientos han mejorado es el hecho de que la avc ha archivado una segunda denuncia referente a los comedores escolares como digo

en el beneficio de la propia administración de otras empresas y evidentemente en beneficio en definitiva del conjunto de la ciudadanía vasca eskerrik asko

que la intervención del representante del pnv me ha dejado

vamos a ver hacía tiempo que no veía yo una respuesta en que el único interés es matar al mensajero

señores del pnv la verdad es la verdad lo diga agamenón o lo diga su porquero

ni el partido popular ni elkarrekin podemos

que hay una corresponsabilidad del gobierno vasco en la situación yo es que de verdad y luego la cantidad de juicio de intenciones mire me voy comprometer a algo

tiene y eso se lo puedo asegurar ninguna conclusión preconcebida ninguna

los juicios de intenciones para hacer política porque vamos a ver es que

como la del amo que habla a los criados os equivocáis del tiempo y el espacio si os metéis conmigo

estáis equivocados porque vosotros solo queréis nuestro mal

eh esto es un parlamento y nadie puede creerse por encima del bien y del mal y creerse por encima del control del parlamento

el representante del pnv con juicios de intenciones me dice sí muy gracioso zikintzeko politika

si alguien lo ha ensuciado y creo que ensuciar no es la palabra porque reprochar algo al pnv no es ensuciar la política porque pnv no es dios

es decir intentar controlar la acción política del pnv no es manchar la política de verdad pongámonos en el plano humano yo ya sé que los jeltzales

y están en un plano divino pero no no vamos a nuestro plan se puede

intentar controlar como es nuestra obligación la acción del pnv

y sin que sea ensuciar la política eso para empezar pero es que quien lo ha dicho es el juez se alude a la fiscalía la fiscalía es muy importante le doy la razón

pero creo que una decisión judicial es un poco superior a una manifestación de la fiscalía y repito

del tribunal superior de justicia del país vasco dice que en esta situación hay una corresponsabilidad del gobierno vasco yo no sé si

lo ha dicho es cierto que en la comisión que usted ha oído igual que yo

sabiendo que aquí fue un error no he pronunciado la palabra fraude o sea que si tenía algo que reprocharme en la comisión haberlo hecho en la comisión

lo que no he dicho no he hablado de fraude he hablado de concertación y luego dice que bueno que de aquí en adelante vale pero que lo de atrás pelillos a la mar

en cualquier empresa a alguien que hubiera producido por estúpido por ignorante por vago

un agujero de siete millónes largos de euros al año lo hubieran puesto de patitas en la calle de patitas en la calle

lo de atrás pelillos a la mar no

que es que el treinta y cinco por ciento

es el perjuicio que se hizo a las familias y solo tenemos contabilizado en esos siete millónes de euros largos solo tenemos

el perjuicio a la administración las familias no merecen que investiguemos bueno y

estamento superior me despido y muchas gracias

los partidos pasan las consejeras y consejeros pasan pero el gobierno permanece y

ni una sola sigla de partido aludida ni una sola sigla de partido aludida porque ha habido tres partidos que han la consejería de educación tres y a ninguno hemos citado el señor latxaga por lo tanto cuando se siente aludido pues evidentemente es traicionado por su subconsciente posiblemente y acaba hablando de corrupción que tampoco ha salido esta palabra en el debate

que es algo que no viene a cuento y etcétera etcétera podía haber tenido la coherencia que ha tenido eh bildu que tuvo un consejero una consejera de

podía haber tenido la elegancia del señor pastor que también tuvo una consejera

ustedes acusan como ha dicho la señora bengoechea al mensajero sí le tengo que decir al señor

inacción eso es lo que han determinado los jueces inacción

las prácticas colusorias se dan cuando alguien mira hacia otro lado y eso es la inacción

y los jueces han determinado han fallado han sentenciado que no hubo ni reacción ni indagación ni consulta ni prevención ni denuncia en contra ha dicho el señor pastor este asunto ya se debatió

una moción se aprobó una moción con tres puntos el segundo

el tercero se insta al gobierno vasco a intensificar los trabajos con los diferentes agentes con el objetivo último de adecuar el modelo de gestión

todavía solo se ha producido la constitución de esa comisión y ni siquiera está completa por lo tanto ni siquiera los requerimientos del parlamento han sido a día de hoy escuchados por el gobierno se han introducido cambios efectivamente en qué han consistido esos cambios

el sistema de gestión a la legalidad que imparte la agencia vasca de la competencia la realidad es que a día de hoy solo una empresa más solo una empresa más está obteniendo la adjudicación

al que ha provocado este enorme agujero patrimonial me gustaría terminar agradeciendo

sociales y sindicales que han estado denunciando este sistema que es injusto no solamente para el perjuicio de las arcas públicas sino para la calidad de los menús y para la independencia o la autonomía de los centros educativos

para que quede claro como ha dicho la señora bengoechea que nuestra única preocupación la de elkarrekin podemos es la de saber cómo las familias han sido perjudicadas y saber si tienen la posibilidad de recuperar el dinero

porque a día de hoy las familias han visto perjudicadas

tramposas que a día de hoy siguen siendo contratadas

y que no han sido perjudicadas en ese sentido siguen dando ese servicio todas y cada una de esas empresas siguen dando ese servicio y que no solamente se conciertan y son un cártel

muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

señor becerra se olvidaba que el sindicato que está allí arriba es lab solamente por concretarlo

porque las empresas no participan en las investigaciones porque las empresas se niegan a venir

no tenía intención de salir porque yo creo que la postura de eh bildu ha quedado clara pero desde el partido socialista me dicen que cambiamos de criterio cambiar de criterio es pensar una cosa y tener que salir a esta tribuna a decir lo contrario como ha pasado en el justo punto anterior eso sí es cambiar de criterio eh bildu no cambia de criterio sigue trabajando de una manera o de la otra al pnv

no vayamos dirigiendo el debate por otros derroteros que nada tienen que ve nadie ha hablado de corrupción nadie ha hablado de esas cosas

pero es que no estamos ensuciando nada lo que estamos intentando es limpiar y yo creo que el partido nacionalista en este caso tiene una especie de obsesión de mirar del ebro hacia abajo quién es más o quién es menos

miremos hacía dentro asumamos la comisión de investigación porque es beneficioso para todos y para todas incluido para el departamento incluido para el gobierno hoy no hablamos quién es más corrupto dejamos de hablar de quién es menos corrupto

es defender a quien no puede hacerlo y en este caso son las familias las que han pagado los menús por encima de lo que era para poder defenderse es que no es nuestra obligación es que estamos aquí para trabajar en eso ni más ni menos yo no lo entiendo de otra manera hablaba de teatralización oye

teatralizar nada es que han desaparecido es que alguien los ha asumido es que seguramente han sido las familias es que los que estamos en esta cámara no hemos sido entonces ya está bien

acepten también esa comisión de investigación por el bien de todos y todas ni más ni menos eskerrik asko

pero no me resisto a hacer algunas valoraciones políticas que no sé si compartirán o no pero en cualquier caso son las nuestras

lo que han hecho ustedes tres aquí es también una práctica de concertación y tiene detrás intereses legítimos yo no digo que no pero están también detrás no se entendería si no que bildu que tiene en su seno a los consejeros que han estado más tiempo practicando de esas prácticas colusorias dos consejeros de eusko alkartasuna que pertenecen a bildu se sume por qué

y yo entiendo que legítimamente tienen ustedes la posibilidad de hacerlo políticamente pero les interesa desgastar al gobierno y el partido popular

para que no sean solo ustedes los que tienen escándalos permanentes

en el ánimo de los firmantes y con podemos en fin como se suben a cualquier carro que les pasa por delante pues es perfectamente

que vean en el asunto en cualquier caso más allá de las legítimas aspiraciones políticas de fondo que están en el trasfondo de toda esta iniciativa porque están

que una propuesta apoyada por bildu por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista no hace tanto tiempo se tire por tierra y se vaya a un escenario donde entonces ustedes

en cualquier caso a mí no me parece mal la comisión de investigación por eso nos vamos a abstener en la votación pero estoy por ver que no se aproveche cada una de las convocatorias de la comisión de investigación como hemos visto en otras ocasiones por desgracia para hacer juicios de valor previas a la reunión y posteriores que poco tienen que ver con lo que luego se discute allí

sino a establecer una imagen de manipulación que es muy mala para el objeto investigado eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

ningún caso que investigar no tenemos nada que esconder absolutamente

la portavoz de eh bildu habla del modelo de gestión de los comedores escolares

y es de la concertación de unas empresas para alterar precios de eso estamos hablando y qué es lo que ha pasado

nos habla de opacidad oscurantismo y que bueno por principios eh bildu nunca se va a negar a la investigación

por principios no se opone nunca a esas labores de investigación tanto usted como algunos cualificados portavoces de su partido lo han manifestado y reiterado

esa mentira no es verdad hace algo más de dos años en esta cámara su grupo rechazo

y el partido popular una comisión de investigación ante las denuncias de que miembros de eta obtuvieron rebajas en sus penas gracias a títulos universitarios conseguidos de forma fraudulenta como vemos es un nuevo capítulo en la ley del embudo la señora bengoechea hace discurso impecable incluso enternecedor a veces

y es un discurso con el cual puedo estar de acuerdo ahora tiene un problema sabe cuál es credibilidad

que la credibilidad es algo que cuando se pierde

se evapora en un abrir y cerrar de ojos señora bengoechea justo lo que le pasa a su formación política por otro lado me cuesta mucho creer que tanto usted como el señor becerra tengan verdaderamente un afán investigador vayan a esta comisión con la curiosidad intelectual que requiere y el hambre de conocimiento que manifiestan hoy aquí saben porque les digo esto

un diario publicado a fecha siete de febrero y bajo el titular el parlamento vasco investigará

en juez y fiscal y dictan sentencia antes de haber escuchado a nadie

señora bengoechea usted dice textual si fuera una empresa privada

esto se consideraría administración desleal de qué estamos hablando señora bengoechea sabe de lo que está hablando usted la administración desleal

como delito a medio camino entre la malversación de fondos y la apropiación indebida

porque usted ya ha puesto el sambenito sobre estos señores

sin escuchar a nadie apenas a los que ninguna instancia judicial y a la fiscalía han llegado

con propiedad con responsabilidad y no hagamos las cosas a la ligera que me da la sensación que es el caso aquí

tampoco se queda corto dice en el artículo que la dejación de actuación por el gobierno supone una connivencia

literal textual ya está sentenciado

otro tipo delictivo por cierto y el gobierno colaborador necesario usted no quiere investigar

que va a elevar a la supuesta omisión de investigación ya la tiene redactada un poco de mesura y responsabilidad

si se va a formar esta comisión de investigación mesura y responsabilidad los hechos no parecen importarles más allá de lo que haya ocurrido de verdad yo creo

la mismísima definición de la posverdad como digo no buscan la verdad no buscan realmente la investigación buscan esto

en mi nombre sino que esta iniciativa conjunta sobre el dictamen de naciones unidas sobre desahucios

es a petición de las plataformas de stop desahucios de euskadi aquí

unas plataformas que junto a otros movimientos sociales recuerdo algunas con especial cariño como el movimiento

guztiontzat que organizamos distintos colectivos juveniles son quienes han empujado han impulsado han exigido los avances que ha tenido este país en materia de vivienda son ellos y ellas quienes han puesto su cuerpo

son ellos y ellas quienes han dado voz a las que querían silenciar

persona en la calle y son ellos y ellas quienes han conseguido que estos parlamentos que estas instituciones se muevan y hagan algún tipo

muy lejos de alcanzar ese sueño y ese derecho básico de una vivienda digna y asequible para todas porque lo decíamos en la justificación

que trajo consigo una de las crisis económicas más largas de los últimos tiempos puso en primera plana una realidad uno de los principales problemas de este injusto sistema

no es otra que la falta de garantía del derecho a la vivienda un derecho que en euskadi

pero que realmente y en lo efectivo no se cumple no se cumple ni con la política de vivienda pública y no se cumple tampoco en el mercado de alquiler privado y lo vuelvo a decir lo decía también en el debate anterior esas medias de ochocientos euros por un piso

que no con esas condiciones qué joven vasco se va a emancipar

en más de la mitad lo que puede cobrar en los trabajos actuales sin obviar además que para bien o para mal tenga que compartir piso

porque yo pregunto la comisión de seguimiento que estaba en ese acuerdo se ha constituido se ha reunido qué trabajo está haciendo el convenio tampoco ha funcionado como demuestran los últimos desahucios

sociales desahucios que no han tenido en cuenta a los jueces que no han valorado los intereses de los menores que estaban afectados

a los que previamente en no todos los casos se ha garantizado una alternativa habitacional

país todos les podemos conocer gato antonia y sus dos hijos en septiembre

el diecinueve de enero dónde están los compromisos del gobierno en este punto

los convenios hay que hacer algo más que la propia firma del convenio hay que ponerlos en marcha no nos podemos hacer solo la foto y guardarlo en el cajón

hobeto antzemateko por todo esto y con el ánimo de llegar a acuerdos acuerdos efectivos además pensamos que vamos a estar vigilantes encima de ellos como estamos sobre el que hace unos meses también consensuamos entre los cuatro grupos que hemos firmado también esta iniciativa acuerdos que en este caso de la mano de esta iniciativa junto

desahucios tenemos y decía que tenemos ánimo de llegar a acuerdos con un objetivo además muy claro

conciso y además pensamos que incluso fácilmente realizable para el gobierno le repito que estaremos encima estaremos encima de la renovación de ese

en el estado español que se produzcan desahucios de primera vivienda siempre tengan una alternativa habitacional y eso lo tiene que garantizar este gobierno vasco estaremos encima para que se trabaje junto a las plataformas para evitar

sin alternativa al igual que se empezó a realizar como decía en alokabide

está para que se incremente también en los presupuestos de dos mil diecinueve el presupuesto para vivienda

y les digo de verdad que espero que este acuerdo sirva para algo porque como decía antes hemos firmado ya recientemente hace unos meses un acuerdo que no se está cumpliendo al menos en su integridad y esperemos que esto cambie por mi parte yo creo que es la última vez que antes de que se cumpla el anterior acuerdo daremos el visto bueno a uno siguiente vamos a ser exigentes

que tenemos que también ver por la parte del gobierno que se están cumpliendo los acuerdos que firmamos en este parlamento porque en el país en ese país que tanta publicidad vemos en ese país del bien común sigue siendo indecente que haya casas

sin casas es indecente que en el país del bien común

nortasunaren parte garrantzitsu bat dela uste dugulako a nosotros nos pareció adecuada esta proposición no de ley nos pareció adecuada porque además

sobre un tema concreto pero creemos que hay muchos más temas o situaciones

por tanto era un tema a abordar era un tema a analizar y era un tema

debíamos de pronunciarnos y no solo pronunciarnos intentar poner políticas y soluciones en marcha por tanto creo que es positivo

que analizar y creo que es la radiografía propia que tenemos en la comunidad autónoma vasca en relación a los lanzamientos hipotecarios creo que comparativamente y lo digo con absoluta sinceridad con otras comunidades autónomas

afortunadamente lo cual no quiere decir que no sea un tema

creo que es algo que nos debe de provocar satisfacción en la medida en que la presión hipotecaria o que tenemos un nivel inferior de emergencia habitacional fruto de los desahucios de los lanzamientos que la presión hipotecaria es menor en la comunidad autónoma no quiere decir

pues hagamos frente a esas situaciones creo que las herramientas que tiene en marcha el gobierno vasco

de lanzamiento sobre todo en lo que se refiere a lanzamientos que afectan a vivienda pública me atrevería a decir que es prácticamente mínimo por no decir inexistente creo que eso da buena muestra de que esas herramientas son perfectamente eficaces pero como le decía esto debe hacer que nos relajemos pues no no podemos ser conformistas en esta cuestión

exista un solo caso creo que existe una gravedad mientras solo exista aunque solo exista un caso existirá una gravedad por tanto

a esa situación de gravedad y tenemos que ser muy serios y muy responsables todos en esta cuestión por tanto creo que

tenemos que ponerlas en marcha e intentar que eso no se produzca y creo que en euskadi tenemos una ventaja al respecto del resto de comunidades autónomas del estado español

la aprobación de la ley de vivienda y esa ley de vivienda es una base fundamental para que estas cuestiones para que estas situaciones no se produzcan no solo para que no se produzcan

a producirse es cierto que todavía el desarrollo pleno de esa ley no es tal no es tal entre otras cosas porque en esta cuestión concreta en todo lo que se refiere incluso a la afección o a la puesta en marcha de políticas de alquiler hay una suspensión por parte de una serie de artículos por parte del tribunal constitucional

con ansiedad que exista un pronunciamiento al respecto y que eso nos permita poder desarrollar plenamente una ley en la que ya se está trabajando en ese desarrollo pleno con la elaboración del decreto que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda entre otros el plan de vivienda yo creo que

mucho y bien y que además no solo se está trabajando unilateralmente por parte del gobierno sino que incluso se está haciendo un trabajo muy intenso con diferentes movimientos y colectivos que desde luego van a dar una perspectiva mucho más amplia van a enriquecer mucho más esos

nosotros tendremos que poner los instrumentos como parte del gobierno para que eso se produzca lógicamente tenemos una ley que es ambiciosa que como decía antes creo que es un hito dentro de la conquista de derechos sociales en este

nos la están intentando copiar pero eso lógicamente tiene que venir respaldado también de un importante esfuerzo económico en los presupuestos es así

todos vamos a tener que ser corresponsables en esta medida pues para poder posibilitar que esas políticas impidan

poner todos los recursos necesarios para que aquellas personas o aquellos sectores de la población más vulnerables o que se encuentran en situación de emergencia habitacional puedan tener con garantía y a la mayor inmediatez posible una solución que les impida

verse en esa situación pues bueno pues bien

no desde que llegamos a esta gobierno durante esta legislatura llevamos trabajando en eso desde el dos mil diez llevamos trabajando en eso desde que patxi lópez era lehendakari y el señor arriola era

del departamento de vivienda porque fue entonces donde se empezó a trabajar

encima de la mesa que hoy es una realidad por tanto tenemos que seguir insistiendo tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir poniendo instrumentos encima de la mesa

posible por tanto estamos de acuerdo en que hay que revisar en que hay que mejorar en que hay que renovar el convenio que tenemos con el consejo general del poder judicial y con eudel lo tenemos que hacer más eficaz más flexible y que se adapte a las nuevas situaciones

para intentar que esa detección temprana sea lo más eficaz posible sea lo más prematura posible y nos permita adelantarnos a unas circunstancias que en algunos casos ya viene sobrevenidas y que vienen ya con una posibilidad de adopción de bastante más complicada por eso creemos que es importante reforzar las políticas de acceso preferente a la vivienda en situación de emergencia habitacional para evitar precisamente

esas situaciones de exclusión social con opciones habitacionales

evitar esas situaciones y también creemos que tenemos un problema y por eso nos parecía muy interesante la propuesta que se hacía en la proposición original

de cambios dentro de la ley de arrendamientos urbanos porque creo que el poder dar la posibilidad a los afectados de presentar

que posibilite analizar todas las alternativas posibles y que en este caso la administración pública en euskadi el departamento de vivienda alokabide pueda adelantarse y en tanto en cuanto se resuelve ese recurso tenga la posibilidad ya

esas situaciones nos parece tremendamente positivo la ley de arrendamientos urbanos debe de ser una ley garantista para la persona inquilina de esa vivienda por tanto nosotros ahí estamos perfectamente

nacional el trabajo con los colectivos lo decía antes está siendo intenso por tanto el punto que se ha añadido me parece perfectamente correcto actualmente en el propio

se está trabajando dentro de un proceso participativo muy ambicioso con esos colectivos y muchas veces se requiere premura se requiere rapidez y tener instrumentos encima de la mesa pero es que muchas veces y no se consigue nada pero es que claro queremos participación ciudadana que esa participación sea amplia

pues vamos a darle tiempo al tiempo vamos a trabajarlo bien para que precisamente esas herramientas y esas aportaciones puedan ser no solo sino incorporadas con la mayor garantía y poder tener la mejor herramienta posible

la satisfacción por el acuerdo al que hemos llegado lógicamente y lo decía ahora mismo estoy de acuerdo en que muchas veces nos pueda

de tener herramientas pero les puedo asegurar que los datos avalan que este gobierno no solo está trabajando con eficacia sino que incluso se está adelantando muchas veces a las circunstancias que están viviendo personas

de emergencia habitacional y no me cabe ninguna duda que el desarrollo efectivo de nuestra ley de vivienda va a marcar un hito histórico en este país y va a ser un ejemplo para el resto de comunidades autónomas y vamos a tener
la mejor herramienta para que estas situaciones no se produzcan eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

señora presidenta buenos días a todos bien yo creo que lo han dicho todos los grupos en esta cámara y nosotros también lo queremos reiterar la vivienda es un derecho fundamental y por lo tanto todos los poderes

tanto en garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda como que poner los medios para intentar que no la pierdan cuando se produce un desahucio por ejemplo y la verdad es que los desahucios han sido una de las caras

de la crisis es verdad que no era un fenómeno nuevo es un hecho objetivo

es cuando empieza un crecimiento exponencial de los desahucios y creo que todos los grupos de esta cámara no solamente hoy aquí en este momento sino también en otras ocasiones en las que se ha debatido sobre el asunto hemos compartido

para cualquier familia perder su vivienda porque no solamente

es perder mucho más es perder vivencias es perder recuerdos por lo tanto creo que todos los poderes públicos tenemos

poner todo nuestro esfuerzo para tratar

y es verdad que quedan cosas por hacer que quedan muchas cosas por hacer pero también es verdad y hay que decirlo así que ni las instituciones básicas ni el gobierno de españa han estado con los brazos cruzados ante situaciones como estas aquí

de los acuerdos y de los convenios a los que se ha llegado desde el gobierno vasco como digo desde eudel desde

y también desde el gobierno de españa el ejecutivo popular

es desde el primer momento que entró no en esta legislatura en la anterior se puso a trabajar

más importantes a los que se tenía que hacer frente y así la primera medida fue el real decreto

de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos estableciendo medidas conducentes a la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender a su pago también se creó el código de buenas prácticas al que voluntariamente

la mayor parte de las entidades de crédito estableciéndose un sistema de fases sucesivas en favor de las familias

vulnerabilidad la normativa posterior ha ido ampliando el ámbito de aplicación y los instrumentos de ese código de buenas prácticas como diré siguiendo esta línea el real decreto ley veintisiete barra dos mil doce suspende temporalmente los

de vivienda habitual de personas en especial vulnerabilidad para de esta forma intentar paliar la situación excepcional de deudores hipotecarios que

de crisis económica habían visto alterada su situación económica y patrimonial y que por lo tanto

tanto este decreto como la ley uno barra dos mil trece encomendaba al gobierno la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas

hipotecario cuando concurriesen condiciones de especial vulnerabilidad el convenio para la constitución de este fondo social de vivienda se firmó entre el gobierno

plataformas del tercer sector las patronales bancarias y treinta y tres entidades de crédito y a partir de ese momento se puso en marcha el proceso de solicitudes de selección y adjudicación de viviendas

una primera ampliación del colectivo beneficiario de estas medidas al incrementar el límite de renta anual elevar el umbral del precio de adquisición de los inmuebles afectados e incluir

que se consideraban vulnerables y el año pasado en marzo concretamente se aprobó el real decreto ley cinco barra dos mil diecisiete fue convalidado

en primer lugar este real decreto incluye la prórroga del plazo de suspensión de los lanzamientos y durante

de las suspensiones de lanzamientos como el código de buenas prácticas manteniendo así la coherencia de ambas medidas para definir el colectivo de beneficiarios se aplican criterios de ingresos familiares la carga que representa la cuota hipotecaria en relación con esos ingresos y circunstancias de especial vulnerabilidad incluyéndose entre ellas las unidades

monoparentales con algún hijo a cargo las unidades

de violencia de género las unidades en las que conviva una persona en situación de discapacidad dependencia o enfermedad grave incapacite para realizar una actividad laboral asimismo los titulares de hipoteca que se encuentren

por desempleo al eliminarse este requisito en tercer lugar se introduce en el código de buenas prácticas la posibilidad de que el deudor hipotecario pueda quedarse en su vivienda en régimen de alquiler un alquiler que se realizará en plazos anuales hasta un máximo de cinco ejercicios prorrogable por otros cinco por mutuo acuerdo de las partes y con un precio que no puede superar el tres por ciento

en el momento del remate determinado según la tasación el gobierno también incluye en ese real decreto una disposición obligándose a presentar en el plazo máximo de ocho meses propuestas para facilitar la recuperación de la vivienda habitual por parte de los deudores hipotecarios

la verdad es que aunque como digo es un drama los desahucios las ejecuciones

han disminuido y un gran número de familias se han podido beneficiar de estas

familias al código de buenas prácticas se han acogido

con restructuración viables de deudas quitas y daciones de pago y el fondo social de vivienda ha facilitado que más de nueve mil familias puedan tener un alquiler asequible y desde dos mil trece

de los lanzamientos las ejecuciones hipotecarias como digo se han reducido según el ine entre julio y septiembre de dos mil diecisiete

de ejecuciones que en el mismo periodo del año anterior y si eso lo comparamos con el peor año en cuanto a ejecuciones hipotecarias que fue el segundo trimestre del año dos mil catorce la caída roza el ochenta y cuatro por ciento

que se hayan reducido las ejecuciones hipotecarias que se hayan reducido los desahucios mientras que haya una

eso hace que las instituciones tengamos que seguir trabajando en el gobierno de españa como digo y también

como se ha explicado aquí también se han tomado medidas para garantizar el derecho a la vivienda de forma inicial y también para cuando se pierde por un desahucio poder hacer frente a esa situación

o no al requerimiento de naciones unidas como también se ha dicho aquí la materia de vivienda es una materia en la que hay corresponsabilidad

las comunidades autónomas y que el gobierno de españa cuando conteste a las naciones unidas en relación con esa comunicación lo que va a exponer es lo que se está haciendo tanto

de las comunidades autónomas de las distintas comunidades autónomas de españa y lo que se está haciendo también en los ayuntamientos que es yo creo que todas las instituciones lo que están haciendo que es trabajar para que

las personas que se ven afectadas primero como se ha dicho aquí a través de una detección temprana se puede actuar previamente y cuando ya

trabajando precisamente para evitar que la situación se produzca nada más muchas gracias

sí que es verdad que ha sido un acuerdo relativamente sencillo

en estos días de esta semana también como ha dicho la señora otamendi contábamos también con la participación

propia negociación por tanto sí quería decir claro que para nosotros para nuestro grupo es vital el acuerdo como lo fue el de hace unos meses

al principio quería remarcarlo que la política de vivienda en euskadi es una política de vivienda la del gobierno vasco y otro tipo de iniciativas

desde hace muchísimo tiempo y nosotros públicamente en años anteriores en la legislatura pasado no estábamos en esta cámara pero sí que al menos

de vivienda con todas las deficiencias que puede tener pero sí que se hizo una valoración positiva de esa pero que tampoco nació

de esta cámara corresponsables de la política de vivienda que se ha hecho en euskadi pero sobre todo también y quería

por haber tenido durante años y años a movimientos sociales a distintas plataformas como las que he mencionado antes y también ahora mismo

desahucios por haber empujado a que nuestras instituciones hayan tomado ese tipo de decisiones

del acuerdo y como decía también en el debate anterior nos quedan grandes retos por delante que quizás no solo pero

es un tema de competencias pero si hubiera voluntad política podríamos empezar a hablar de ello que es una realidad a la que no estamos llegando

desde el alquiler público todavía nos quedan muchísimos años para garantizarse si siguen las partidas presupuestarias como hasta ahora para garantizar el derecho a un alquiler

un alquiler que sea sostenible con una vida digna con una vida que no se tenga que destinar más de la mitad del sueldo a pagar ese alquiler sino que haya dinero y recursos para disfrutar de la propia vida que para estamos

creo que tenemos que empezar a meterle mano a esa gran especulación del mercado de alquiler privado creo que es un reto importante que tenemos que empezar más que empezar tenemos que empezar a debatirlo y ponerle medidas porque solo por lo menos

que ha presentado el gobierno vamos a tardar décadas en poder satisfacer el derecho

señor martínez le agradezco que valore positivamente que tengamos una ley de vivienda que se haya podido sacar adelante y que espero que

dentro de poco podamos tener un desarrollo normativo que nos permita tener herramientas suficientes para poder trabajar como este gobierno tiene voluntad de hacerlo y como en la medida de lo posible y de las herramientas que cuenta ya lo está haciendo

el hecho de que usted valore positivamente que tengamos esta ley y el trabajo que se ha hecho no deja de ser una buena manera de reconocer que ha habido gobiernos anteriores que supieron ver la realidad

comenzó a trabajar no podemos decir lo mismo de otros gobiernos y de otros responsables

posibilidad de poner herramientas y de poner políticas encima de la mesa cuando verdaderamente este gobierno contaba con muchos más recursos económicos para hacer una

basada en el alquiler en el favorecimiento del acceso a la vivienda de los jóvenes de colectivos desfavorecidos pero sobre todo de poner encima de la mesa políticas de alquiler se dedicaron a construir viviendas y a construir viviendas

cosa que ahora ustedes achacan a veces a algunos gobiernos que únicamente se dedican a la promoción de vivienda

en marcha políticas de alquiler políticas además

concretos que entendemos que es lo que se debe de hacer que verdaderamente son políticas eficaces para cambiar de alguna manera el concepto que esta sociedad tiene

relevantes que esas políticas son verdaderamente eficaces y que suponen un antes y un después en la manera de hacer política no solo aquí sino a nivel

un consejero que haya decidido poner en práctica esas políticas hay otros que igual no pueden decir lo mismo y yo qué quiere que le diga a mí me alegra mucho

preocupado por esta cuestión que se preocupe y que además nos traiga a esta cámara proposiciones no de ley me parece maravilloso y además qué quiere que le diga además de parecerme

se las apoyo pero muchas veces antes de hacer un discurso que me parece muy bien que es correcto que se lo compro y que además se lo he apoyado aquí hay muchas veces conviene vamos a decir que reforzar su posicionamiento con datos y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que haya venido aquí a hacer una serie de

comparto pero que no hayan venido avalados de datos yo he dado algún plumazo pero yo le pediría por favor que si va a tratar estas

todavía no lo ha hecho todas las preguntas que ha registrado en esta cámara sobre esta cuestión ninguna ha sido referente sobre los lanzamientos hipotecarios en vivienda pública que haya podido hacer este gobierno ni

no hable de oídas hable con datos tangibles y cuando hable de las políticas de este gobierno lo hagan con propiedad le invito a que lo haga

y en el ejercicio democrático su labor como parlamentario creo que es algo muy bueno contrastar los datos que tenemos para observar la realidad y después poder hablar con propiedad que como digo le compro sus argumentos se lo digo de verdad y creo que es

mientras solo exista un único problema de una persona que puede quedarse en exclusión social

un lanzamiento porque no tenga una alternativa habilitacional este gobierno tendrá que tener un compromiso por tanto me alegro muchísimo de que hoy hayamos llegado a este acuerdo

que impida que situaciones de este tipo se produzcan sino que incluso todos los pasos que demos
los sigamos dando por unanimidad como hasta la fecha muchas gracias eskerrik asko andueza jauna berasaluze andrea euzko abertzaleak

muy brevemente bueno siempre

lo de o pedir todas las competencias o sino señalar

que es que lo que no funciona es porque es competencia de fuera del gobierno vasco yo creo que como he dicho las he expuesto antes las medidas que ha tomado el gobierno de españa también está tomando medidas por ejemplo para la modificación de la ley de crédito inmobiliario para precisamente paliar las cuestiones

que se hacía referencia aquí pero lo que muchas de las cuestiones relativas a vivienda son competencia aquí

paliar esa situación es competencia de aquí y nosotros reiteramos lo que dijimos en el debate de la ley de vivienda hay partes de esa ley de vivienda con las que estábamos de acuerdo y partes que no estábamos de acuerdo pero también le digo

completo de esa ley de vivienda que está tardando en desarrollarse y simplemente para solicitar si es posible la votación de la enmienda por puntos querríamos votar de manera separada

el tres y el cuatro luego

muchas gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días a todos

vitoria esta mañana se han encontrado con la situación un poquito complicada en las carreteras

ayer y ha ocurrido esta semana y fue ayer cuando oí en un informativo de radio local cómo avisaban de que la diputación foral de álava había activado el plan de viabilidad

un enorme número de máquinas quitanieves de máquinas que esparcían sal así como

y añadía el locutor de radio que también se habían puesto en marcha dos patrullas de miñones que iban a estar controlando las labores de apertura de todas las carreteras del territorio

es un número muy bajo y que lo habitual antes era un número

ante situaciones extraordinarias climatológicas pues despliegues extraordinarios de medios por parte de la diputación foral de álava qué es lo que ocurre que ahora no hay efectivos

o simplemente controlando el tráfico y asegurando de que todos los ciudadanos que salen que necesitan salir a la carretera estos días lleguen a su destino de la misma manera que este fin de semana nos encontraremos con todos los montes

por desgracia bien es sabido que es el momento en que los cazadores furtivos se ponen las botas y hacen su agosto porque siguen simplemente las huellas en la nieve y esquilman

los miñones la sección de miñones o el cuerpo de miñones de la diputación foral de álava porque no tiene apenas efectivos y el grupo gama la policía medioambiental

lo hace muy de vez en cuando por eso en diciembre interpelamos a la señora consejera de seguridad aquí presente para ver cuándo se iba completar la relación de puestos de trabajo de la sección de miñones para llegar a los cien efectivos

de agentes como está prevista en esa rpt y la señora consejera no nos respondió con claridad nos hizo un exhaustivo

recuento de todos los medios materiales muy necesarios con los que se ha dotado al cuerpo de miñones

medios materiales cuando lo que nos faltan son medios humanos y lo que le estábamos pidiendo era que efectivamente se completara la rpt

se van a jubilar veinticuatro agentes vamos a contar con veinticuatro agentes menos porque van a acceder a la muy merecida jubilación que se han ganado

de servicio y entonces se quedaría la plantilla entorno a los sesenta agentes un sesenta por ciento del total lo que impediría el desarrollo efectivo de los cuatro grupo de trabajo que tiene asignada en este momento

de que estuvieran en marcha todos los grupos de trabajo nos vemos obligados a presentar hoy esta iniciativa que la mayoría de la cámara va apoyar porque entendemos que hemos llegado a un acuerdo que es un acuerdo sencillo y un acuerdo necesario un acuerdo sencillo porque señora consejera

nada nuevo no solicitamos partidas presupuestarias de difícil acceso o que no existan simplemente solicitamos que se sigan haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora nadie pone en duda al contrario la profesionalidad de los miembros

y todo el mundo está de acuerdo en que su efectividad en el trabajo es muy alta y por lo tanto lo que le estamos pidiendo es que eso pueda seguir siendo así la respuesta era contundente

los agentes de la ertzaintza completaremos el grupo de miñones pero señora consejera si no se toman medidas inmediatas nos encontraríamos con que en diciembre de este año

no vamos a contar con un número aproximado de los cinco mil agentes sino que estaremos mucho más cerca de

era que se completara igualmente bien no nos quiso responder entonces y hoy le traemos esa iniciativa algo insisto sencillo que se sigan haciendo las cosas como están si se les dota de nuevas funciones bueno pues que tengan

que las puedan cumplir y un acuerdo necesario en la comisión de medio ambiente se han visto efectivamente y se ha oído durante meses a muchos agentes

de la precariedad de medios para luchar contra los delitos medioambientales y

grupo una pequeña sección o un pequeño grupo de trabajo que lo que hace es precisamente luchar contra

solucionar las denuncias que se presentan en esos servicios no se pueden hacer labores de prevención porque no hay agentes y en esa comisión precisamente lo que se ha puesto en valor es el grupo de trabajo gama del cuerpo de miñones que ojalá en los tres territorios contáramos con esos efectivos

acabo o conseguir los mismos fines que se estaban consiguiendo en álava pues lejos de que ese ejemplo se traslade a otros territorios históricos a gipuzkoa y a bizkaia lo que hacemos es

medioambiental pueda seguir ejerciendo sus funciones en álava por eso entendemos que ese acuerdo que le estamos

y además que también se respeten es el último punto del acuerdo de los tres grupos de eh bildu y de podemos con el grupo popular el proponente solicitamos que se respete la flexibilidad horaria con la que contaban hasta ahora

soliciten el traslado a esa unidad no le ponemos ninguna fecha señora consejera le pedimos que lo haga nada más y que se vayan cubriendo

más que merecida jubilación de todos esos agentes que se van a retirar de los veinticuatro que lo van a hacer y además cubrir las plazas que en este momento no están cubiertas yo no sé si porque la diputación foral de álava no se lo pide o porque usted no puede o no quiere dárselo

en que una vez que se manifieste la mayoría parlamentaria en ese sentido usted tome las medidas adecuadas para que no tengamos que hablar de esta situación de nuevo
desde esta tribuna muchas gracias eskerrik asko arbulo jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on denoi como ya ha explicado el señor arbulo

de populares vascos sobre la sección de miñones de álava desde elkarrekin podemos estamos de acuerdo

donde se insta a cumplir con el compromiso entre instituciones del gobierno vasco y la diputación foral de álava para dotar

por lo que se propone completar la plantilla de la sección de miñones de álava hasta los cien efectivos previstos en la rpt para facilitar la gestión de los cometidos actuales

cuando hablamos de las funciones y tareas que han de llevar a cabo los miñones que son más que las citadas en la propuesta inicial referidas a medioambiente y transportes en opinión de nuestro grupo parlamentario

e incluir tareas de policía fiscal protección de menores control de urbanismo y defensa del patrimonio histórico según las competencias forales vigentes

el origen del cuerpo de miñones se remonta a la baja edad media cuando en un contexto de grave conflictividad socio política

cuyo alcalde de hermandad era el encargado de ejercer justicia para ello disponía de uno o dos hombres armados para el mantenimiento del orden público en toda álava

desde entonces las funciones de los miñones han ido desde la represión contra los liberales en las primeras décadas del siglo diecinueve hasta la prevención de sublevaciones carlistas o la persecución del fraude fiscal

y principios del siglo veinte en mil novecientos treinta se produjo una reorganización del cuerpo que quedó estructurado en tres secciones miñones recaudadores de impuestos miñones y miñones forestales lo cual se mantuvo durante la dictadura el cuerpo de miñones siempre ha sido un cuerpo civil dependiente de la diputación foral de álava aunque en la actualidad y tras el estatuto de autonomía y con la creación de la policía autónoma la ertzaintza los miñones siguen siendo policía autónoma hasta el año mil novecientos noventa y dos

se convierten en una sección más de la misma con doble dependencia una dependencia funcional de la diputación foral de álava y una dependencia orgánica

por tanto a partir de la última promoción de miñones allá por la década de los ochenta ya no ha habido más promociones de miñones propiamente dicho sino que todos son

se puede optar a formar parte del cuerpo de miñones en la actualidad la sección de miñones presta sus servicios en cuatro áreas de actividad área de apoyo a medio ambiente área de inspección de transportes y carreteras área de seguridad institucional autoridades y patrimonio y centro de coordinación

y con agencias externas en materia de emergencias el cuerpo se ha mantenido exclusivamente de los fondos provinciales su existencia se ha visto directamente afectada

de un número u otro de sus componentes y hasta en su desaparición y subsiguientes nuevas creaciones según circunstancias del momento

como ya ha explicado muy bien el señor arbulo hemos llegado a un acuerdo firmando una enmienda de transacción junto con el grupo proponente

no hemos conseguido llegar a un consenso con los partidos de gobierno que van a mantener su enmienda la plantilla según lo previsto por las rpt de la ertzaintza es en efecto de ocho mil agentes

y cada día menos contando con jubilaciones por edad o enfermedades algunos fallecimientos contadas excedencias

o por expulsión también es cierto que la renovación ha tenido la dificultad de la viabilidad legal de las convocatorias pero no todo es culpa del gobierno central

la delegación del gobierno en la comunidad autónoma y otros enlaces del pp con el partido nacionalista vasco indicaron al gobierno

para conseguirlo las autoridades nacionalistas no quisieron cumplirlo cuando otras políticas austericidas han sido seguidas en la mayoría de las actividades

para el victimismo frente a madrid y el resultado como se ha visto

cuando les ha interesado y no podían aguantar más las carencias de agentes en la macroestructura actual no podemos hacer un uso partidista de las instituciones

con más jubilaciones que incorporaciones en un proceso diacrónico divergente esa carencia de agentes repercute desigualmente

hay unas que están más completas que otras dependiendo de las prioridades del gobierno vasco es más

consideramos que se debiera de completar totalmente estos cien además proponemos que se proceda a un ajuste formando ya a agentes para las competencias de policía fiscal en conexión con la inspección fiscal foral

administrativista y que persigue escasamente por la vía penal los ricos hacen complementarias y los rateros van a la cárcel otra que sea de función de protección de menores que hoy en día existe una problemática en la actualidad

en la planificación normativa foral y en la defensa del patrimonio histórico artístico de ámbito foral también habría que estudiar las competencias forales a fondo junto a su estructura departamental

pensando no en la ampliación de la intervención policial sino en la persecución efectiva de las transgresiones que perjudican el interés público en promoción del bien social como ya hemos dicho las funciones deben ampliarse

y patrimonio histórico seis agentes al menos hasta una más completa revisión de las competencias forales susceptibles de precisar una capacidad coercitiva directa

la necesidad de reforzar al grupo de apoyo de medio ambiente gama un grupo especializado de miñones en álava dedicado a velar por el buen estado de nuestro medio natural

mala utilización de los espacios naturales son solo algunos de los problemas a los que tienen que hacer frente en su día a día junto a otras infracciones que vulneran el cuidado y la conservación

y la diversidad medioambiental en euskadi para finalizar hacer mención a que las condiciones laborales sigan siendo flexibles instar a la ampliación de las funciones a las diputaciones que es quien compete e insistir en la buena gestión del servicio para que se protejan el interés público y el bien social y que desde la formación

y la cercanía y colaboración con la ciudadanía se siga velando por el mundo rural y natural en los tres territorios que conforman nuestra comunidad autónoma es imprescindible desde las instituciones que cuidemos de nuestro entorno y de nuestro patrimonio mila esker

lo intentaré explicar con un silogismo los delitos de medioambiente no son perseguidos adecuadamente el cuerpo de miñones cuenta con ocho agentes del grupo de apoyo al medioambiente de por sí pocos

los delitos de medioambiente se van a perseguir todavía peor todavía con más deficiencia todavía con más precariedad por lo tanto una cuestión de necesidades de actuación entre

de delitos e infracciones medioambientales y recursos insuficientes y según algunos datos que nos están ofreciendo cada vez más escasos y cada vez más precariamente cubiertos yo creo que este es el problema que enfrentamos en las explicaciones que dio la señora beltrán de heredia en la interpelación del señor ruiz de arbulo hace un par de meses

que por otro lado no se habían demandado y que por otro lado está todo cubierto

cuántos agentes completaban la rpt y si estaba la rpt cubierta y la señora

ni se ha modificado ni se modificará porque no vemos ninguna razón para ello ni se modificará parece que ese es el enganche para la iniciativa que hoy traemos no sé

del debate de la discusión que estamos teniendo en la comisión de instituciones seguridad y gobernanza porque tal vez esas carencias que se nos están marcando ahí sí que nos indican que se debiera de modificar pero nunca a la baja estos recursos

a la alta y yo puntualizaría que dependiendo de las necesidades que se apunten en ese debate de la comisión tal vez se derive que precisamente

del departamento pero no de nueva creación sino tal vez detrayendo de otros servicios que estén mejor cubiertos o que tal vez no tengan tanta prioridad

que es decidir sobre las prioridades en cuanto a los números

la previsión de futuro la fluctuación que habría en el futuro explicaba que el índice de vacantes general en la ertzaintza es del siete por ciento y que

índice era similar pero parece que los números no concluyen con esta afirmación beltrán de heredia decía que la plantilla era de noventa y dos entonces en diciembre y había perspectiva de que otros dos se jubilaran

sobre cien eso quiere decir que el índice de vacante sería un diez por ciento

en febrero de dos mil diecisiete ramiro gonzález diputado general de álava

muy airado además al pp cuando trajo este punto diciendo que había ochenta y ocho agentes un doce por ciento de bajas

el señor arbulo dice que las jubilaciones conllevarán que se baje a sesenta efectivos

tampoco se ha rebatido ese punto si hay un sesenta por ciento de efectivos es decir un cuarenta por ciento de vacante comparemos con ese siete por ciento de vacante

llegamos a entender y es por qué se someten o se condiciona el cubrir estas bajas de los miñones a que se llegue

porque no veo el porqué para nosotros no es cuestión de cumplir con ese número como si fuera un número emblemático como si fuera un tótem un fin en sí mismo

la cuestión no es ver dónde hay que invertir perdón para nosotros la cuestión es precisamente ver dónde hay que invertir esos recursos ante qué necesidades y se está demostrando que las necesidades de seguridad que cubren los miñones son reales los recursos específicamente en medio ambiente son todavía escasos

sometido a que se complete la plantilla de la ertzaintza

los grupos que sostienen al gobierno no estaban dispuestos a llegar a una transacción que por otro lado hemos llegado los grupos

salga aprobada por la cual además velaremos

iniciativa que presenta el señor ruiz de arbulo me crea una primera duda y es si realmente estamos ante una moción

ante una adivinanza si fuera ante una adivinanza le falta la rima y por lo tanto quizás en su intervención de réplica lo pueda mejorar en realidad no estamos ante un problema que nace con la interpelación que le hace a la consejera sino que ya desde hace año y pico

le preguntaron al diputado general le preguntaron a la consejera de seguridad

en qué situación se estaba y cómo se podía resolver lo tenía usted perfectamente detallado en las diferentes interpelaciones el objetivo de cien miñones

es un objetivo irrenunciable por parte de este gobierno además la forma de resolverlo es mediante ofertas públicas de empleo como usted bien sabe estas han estado intervenidas durante muchos años por la acción política que ustedes llevan en españa en relación con la congelación de las plantillas

estimada y pactada entre el gobierno de españa y el gobierno vasco el número de ertzaintzas en la medida que se complementara los ocho mil

el número de miñones y además también para abundar más en detalles se le explicaba cómo se iban dotando a medida que se iban jubilando

vacantes en la sección de miñones cómo se proveen estas y ya se le explicaba que era un acuerdo con los sindicatos por una serie de méritos en relación a un criterio de antigüedad etcétera es decir lo tenía usted absolutamente todo para tener

cuál era el procedimiento para llegar a este objetivo bueno aun así usted ha querido insistir con convertir esa interpelación

con lo que se pregunta aun así se quiere mantener la iniciativa pues casi es mucho mejor venir directamente

nos ahorramos tiempo y no tenemos que estar aquí dando la matraca pero bueno usted plantea la moción y la moción en cierto modo

es mejorable precisamente por eso nosotros hacemos una enmienda porque es mejorable pero es una mejora que va muy en la línea de lo que usted plantea

el diputado general y también la consejera de seguridad bueno hasta ahí todo más o menos bien pero

que dice que es transaccional que no sé lo que transacciona

se parecen como un huevo a una castaña el suyo con el de podemos y con el de bildu pero bueno probablemente usted tiene la oportunidad de

qué elementos les une y quizás así lleguemos aunque sin rima a aclarar cuál es la adivinanza a la que usted nos ha querido

y entonces por un lado extrañamente plantea la referencia

sabe que bildu está por reducir drásticamente

más del veinticinco por ciento que dice que sobran agentes en el país vasco por eso a usted le dice que para llegar a un acuerdo

en lo cual siguiendo con lo de la adivinanza no sé si pretende llegar a cien en el cuerpo de miñones

personal de la administración general en fin me imagino que la única forma de dotar el cuerpo de miñones en su cifra de cien será con ertzainas por tanto es dudosa o difícil de entender esta

sobre quien solamente le preocupa en el aspecto de la seguridad lo medioambiental

y que sin embargo con usted accede bajo condición de quitar la referencia a la ertzaintza

además en esa enmienda transaccional ustedes plantean que la diputación foral tiene

la seguridad no fuera única en el país vasco más allá de que haya una sección de miñones que tiene unas competencias determinadas pero usted acepta llegar a esa transacción y para poder diferenciarse del gobierno con el que parece que quiere diferenciarse a costa de lo que sea usted acepta ese término de auto organización que nadie sabe lo que quiere decir porque las tareas de seguridad las

de la forma que cree oportuna implementando donde hace falta moviendo a donde hace falta etcétera en función de la casuística que en seguridad pueda producir pero bueno como a usted lo que más le importante es diferenciarse del gobierno accede a introducir ese término que es absolutamente confuso totalmente impropio de alguien que representa una opción política que este tipo de cosas las suele llevar muy ordenadas y organizadas y sin embargo

tendrá las competencias que según la auto organización de la diputación quiera derivar sobre ellos

en fin un planteamiento absolutamente absurdo además plantea un elemento de flexibilidad laboral nadie sabe lo que es usted hablaba aquí tímidamente del horario pues efectivamente el que va a hacer determinadas labores medioambientales no sale por la noche sale por el día

como es razonable en función de las necesidad y en función de en qué momentos del día hay que hacer cada cosa

razonablemente está organizada está resuelta por la organización del propio

todo eso estaba perfectamente establecido y perfectamente ordenado sin embargo usted ha preferido esta

ya digo le lleva a ninguna parte le lleva a la confusión y yo tengo la sensación de que este asunto

a una apariencia de más alavesista que nadie a ser más alavés que celedón o si ha sido para jugar con los sentimientos con el cuerpo de miñones con la foralidad

desde hace muchos años y que recuerda mucho a aquellas soflamas de unidad alavesa más que a un partido que en fin el asunto de seguridad lo suele llevar muy medido como muy atado como muy rígido

y entra ya en consideraciones y en conceptos que usted en esta tribuna sería incapaz

ante eso entenderá que hemos tenido la necesidad de mantener la enmienda reciba asesoramiento le doy tiempo eso es ya le han dado las instrucciones en fin hemos tenido la necesidad de mantener

porque en la enmienda está perfectamente delimitado que queremos que haya cien que queremos que haya ofertas públicas de empleo

y que de esa medida se irán cubriendo y que las competencias ya están resueltas

los de los miñones y que la organización de la seguridad corresponde al departamento de seguridad esto que usted debería de abrazarlo porque sabe que es la lógica y la razonabilidad en un partido de gobierno pues hoy por alguna adivinanza sin rima

si tiene más explicación explíquelo pero sobre todo explíqueselo a los suyos

hasta el punto de que cuando yo le estoy interpelando por lo que ha hecho

fue más allá manifestó compromisos y su respeto hacia los miñones de forma personal y también como cabeza del departamento del gobierno vasco

de hecho los miñones son un símbolo propio de araba querido por la sociedad alavesa con total arraigo en el territorio de origen foral con una naturaleza y régimen singular

y nuestro partido y por ende este grupo parlamentario y también

la organización institucional particular que tiene araba y por ello los miñones usted señor ruiz de arbulo estaba preocupado y parece que sigue preocupado

por que se cubran las plazas de miñones la consejera ya le contestó el día uno de diciembre y nosotros le volvemos a decir en la enmienda

que se vaya completando la sección de miñones hasta los cien efectivos que tiene previsto actualmente en la rpt en la relación de puestos de trabajo

la plantilla de la ertzaintza porque no puede ser de otra forma la cobertura de

de los cien efectivos de los miñones no puede estar sino condicionada

su no previsión de modificar los inefectivos de la rpt que era otra de sus preocupaciones y cuándo cuándo se da esta cobertura que insistía usted tanto pues ya se le contestó habrá cien miñones cuando haya siete mil novecientos ertzainas y por qué esta condición

porque como ustedes saben los miñones son

los miñones es un cuerpo único desde el uno de enero del noventa y tres a través de la ley de policía vasca que no podemos olvidar de vez en cuando

y de provisión y por otro lado tienen como ya saben dependencia funcional de la diputación

su provisión no se pueden analizar en ningún caso al margen de los de la ertzaintza no se puede desvincular en cuanto a las condiciones de trabajo ustedes hacían referencia en la iniciativa original no se hacía referencia

hacen una referencia a las condiciones de trabajo las condiciones de trabajo de los miñones son

y ustedes ahora incluyen la palabra flexibilidad de condiciones de trabajo que no sabemos qué quiere decir flexibilidad en las condiciones de trabajo es verdad que nos ha resultado sorprendente sobre todo por su parte señor ruiz de arbulo es una cuestión que planteaba bildu pero

y usted ahora habla solo del horario es verdad que el horario es parte de las condiciones de trabajo pero en la enmienda en la que ustedes han firmado hablan de condiciones de trabajo y eso qué es eso es una indeterminación y quien de ustedes no estar sometido a la norma y pedir una flexibilidad

nos resulta sorprendente en cualquier caso las condiciones de trabajo de los miñones de la ertzaintza y de cualquier funcionario están regladas y definitivamente

que se pueda garantizar un buen funcionamiento en los servicios por lo tanto crear falsas expectativas

en cuanto a las jubilaciones que ha nombrado usted somos plenamente conscientes que se van a producir jubilaciones se van a producir jubilaciones en los miñones se van a producir jubilaciones

de todas las administraciones públicas hacer frente al relevo generacional y sí somos conscientes

se da se va a dar esta circunstancia igual con una mayor incidencia

para su acceso y por ello la media de edad

somos conscientes la gente se va ir jubilando claro y el gobierno irá dando soluciones

no sé quién que es mucho mayor que no salen las medidas yo creo que está dentro de la media en este momento ayer a siete de febrero había ochenta y nueve efectivos

es un ochenta y nueve por ciento hay algunas unidades de la ertzaintza que tienen más y hay otras que tienen menos pero no está en una situación peor que el resto

no se pude vender que hay un abandono porque hay un mantenimiento continuo de

miñones esto no está dejado y esa media ochenta y nueve noventa noventa y dos es la que se ha mantenido en la última década incluso en otras épocas

esa media ha sido constante en cuanto a la previsión de puestos de trabajo ustedes quieren desvincularse continuamente de las ope nosotros entendemos que es la solución definitiva han hablado de alguna que el gobierno busque otras fórmulas otras fórmulas

provisionales pero el gobierno debe garantizar un equilibrio adecuado entre las unidades es verdad que se puede acudir

y se seguirá acudiendo pero no es la solución definitiva la solución definitiva los cien efectivos van a llegar con la ope porque

una unidad u otras unidades porque nos miñones tienen que tener cien claro que tendrán cien pero cuando el resto estén también completas y el gobierno debe mantener una

debe garantizar ese equilibrio en cuanto al retraso se ha nombrado ha habido un retraso de cara a

recursos interpuestos por madrid que

usted dice no es que el veto ya se ha levantado bien el veto se ha levantado pero la recuperación tarda es un proceso

ese daño que ha producido ese bloqueo también lo han sufrido los miñones ha sido general lo ha sufrido la ertzaintza pero también los miñones

y aunque usted señor arzuaga ha dicho que la consejera en la interpelación habló de los medios materiales cuando nadie le había preguntado si repasa la pregunta de la interpelación

y la consejera también fíjense que una muestra del interés

parque móvil por lo tanto hay una preocupación y una ocupación en ello por otro lado ustedes han querido centrar parte del debate en las funciones

están funcionalmente son funcionalmente dependientes de la diputación foral de álava

las cuestiones internas en relación a estas funciones este régimen especial lleva a que la diputación foral de álava y el gobierno vasco deban mantener una coordinación permanente

a los miñones en relación a las tareas de protección de medioambiente que ustedes han insistido la competencia

las otras tres que son todas consideramos que todas son importantes

con los guardas forestales y medioambientales de la diputación con las fiscalía

es una competencia compartida no quiere decir que bueno que reconocemos la labor y profesionalidad con que los miñones

de funciones por todo ello compartimos la necesidad de ir completando la sección de miñones hasta los cien efectivos compromiso firme del gobierno vasco todo ello en la medida en que se vayan cubriendo también el resto de plantilla de la ertzaintza sin poder desvincular

y de este asunto no se habló en diciembre es porque ha sido en enero cuando se han producido esas modificaciones no todos

no todos tienen ordenador los mismos grupos de trabajo y la sección de miñones tenía una forma de trabajar hasta el treinta y uno de diciembre y ha variado en estos momentos es diferente y esa fórmula nueva que se ha implantado no se ha hecho de acuerdo con los representantes de los trabajadores y no les gusta porque hace que la sección de miñones sea mucho menos atractiva para

optar a pedir su plaza allí una vez que cumplan el resto de los requisitos por eso nos interesa que se respete ese sistema antiguo es así de sencillo usted misma nos ha dado el dato había ochenta y nueve miñones en la plantilla de los cien que debiera haber ese once por ciento que falta por cubrir está lejos del siete y sean veintitrés o sean veinticuatro las jubilaciones para este año nos lleva más cerca de una tasa del treinta y cinco cuarenta por ciento que se aleja muchísimo más del siete por ciento

precisamente por lo que hoy hemos traído esa iniciativa aquí para pedirle al gobierno que ponga fin a esa situación yo siento mucho haberle decepcionado señor prieto y que mi iniciativa

usted a mí no me ha decepcionado lo más mínimo es más me ha traído a la memoria aquellos viejos tiempos en los que debatíamos en las juntas generales por cierto con dos miñones en la puerta del salón de plenos yo no voy a entrar a ese estilo provocador

propio de sus intervenciones y quisiera precisamente llevarle al sentido contrario que es el sentido común el sentido común es lo que ha unido a estos tres grupos para intentar sacar adelante esta iniciativa

completamente diferente pero que se han puesto de acuerdo para que por favor en la sección de miñones se sigan haciendo las cosas como hasta ahora y se dote del personal

cosa más sencilla imposible que redacto mal y le hago incomprensible la redacción de la transacción pues es posible

e intentaré escribir mejor la próxima vez y de una manera más clara pero esa es la explicación que le doy y usted está a tiempo de votar porque es que estoy seguro de que a usted

y mucho la situación del cuerpo de miñones y a usted le preocupa y mucho que no puedan llevar a cabo sus funciones por falta de personal por eso le insto señor prieto a que vote a favor del acuerdo de transacción que gracias a la flexibilidad
del señor arzuaga y de la señora garcía hemos llegado entre los tres grupos nada más eskerrik asko

rpt lo que pasa es que eso no se compadece de lo que ustedes están diciendo en su enmienda porque ustedes lo que vienen a decir es que se conforman con el siete por ciento de vacante ustedes lo que vienen a decir es que asumen que hay un siete por ciento de vacante al menos porque como dicen que ese

lo trasladan también a la plantilla de miñones al menos digo porque en la realidad la señora larrauri nos decía que es el once por ciento pero vuelvo a decir el señor ruíz de arbulo ha estado hablando de las jubilaciones que se tienen que enfrentar ha dicho que

y nadie se lo rebate y tiene lógica la moción

revolucionaria pero lo que estamos diciendo es que no aceptamos ni un once por ciento ni un siete por ciento

y es verdad que algunos de nosotros hemos puntualizado en un servicio tenemos más interés que en otro y nosotros vuelvo a decir es delitos medioambientales porque está

atendido y si encima esta plantilla se ve todavía más minorizada se van a atender peor y cuando es cierto que los distintos y los opuestos se ponen de acuerdo la pregunta es por qué ustedes han tenido la dificultad para ponerse de acuerdo con nosotros cuando además al principio al menos tenían voluntad para ello

el señor prieto nos dice que esto no lleva a ninguna parte bueno pero es una decisión mayoritaria

y la señora larrauri también decía que es esta la situación

y si el señor ruíz de arbulo y yo tenemos algo tenemos algo en común es que hemos visto algunas otras decisiones que se ha tomado en esta cámara

y yo lo que quiero poner en valor es que hoy hemos tomado una decisión y es cien miembros

efectivos en la rpt de la plantilla de los miñones y que se lleven a efecto y cuando he terminado la anterior intervención he dicho que velaremos porque esto se lleve a la práctica porque vuelvo a decir porque tenemos experiencias pasadas en las cuales se ha decidido una cosa y se ha hecho otra y yo creo que

y no acepta ni situaciones ni contextos ni amoldarse

vamos a tomar una decisión espero que se cumpla eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialistak

presidenta señor ruíz de arbulo no se irrite ni se enfade

encajador yo le he interpelado una serie de cosas que usted ha sido incapaz después aquí de contestármelas oiga si yo le pregunto no contesta en fin le interpelaré y si

que es la acepción de provocador bueno este es su problema pero qué tiene que ver usted en aspectos de organización de la seguridad con bildu yo creo que usted ha querido simplemente

levantar una bandera como que son los mejores defensores de los miñones en álava y para eso

cualquier acompañante su objetivo era tener una mayoría con esa bandera pero para eso ha tenido usted que dejar muchos pelos en la gatera usted ha tenido que esconder

porque no hace esa referencia yo le digo por qué en la enmienda

pues porque hay una exigencia de bildu para poder llegar al acuerdo y para poder llegar a esa mayoría porque

y ustedes sin embargo sí ustedes están de acuerdo pero como les importa más discrepar que otra cosa con el gobierno

le suaviza su responsabilidad por haber estado congelando plantillas y por haber estado congelando empleo público durante muchos años por su nefasta política en el gobierno de españa y por eso hoy hay carencias de seguridad en

porque hay cientos de bajas si se lo decía el señor arzuaga en su intervención aquí si en realidad le sobran no

pero no le sobran uno ni diez le sobran dos mil por lo menos

cien miñones que se encarguen solamente y fundamentalmente tal como ha expresado en su intervención de los aspectos medioambientales

y hay carencias en los aspectos medioambientales y en tantos delitos que se han hecho antes y que están sin esclarecer y que todavía siguen abiertos y vivos para esos también falta investigación pero si fuera por el señor arzuaga si fuera por bildu e incluso igual hasta estarían dispuestos aceptar que hubiera doscientos miñones o quinientos miñones para los delitos de

y todos sabemos el porqué y usted entra en ese relato y usted

y eso es para afearle esa conducta política porque por intentar tener una bandera de discrepancia con el gobierno acepta lo que es infumable para usted y lo que es infumable incluso para el gobierno de españa

en el país vasco y esto es una irresponsabilidad política que usted hace y yo se lo digo eso le parece una provocación pues muy bien a mí me da exactamente igual pero es una irresponsabilidad lo que usted hace

y asume en la enmienda que se pueda autoorganizar en materias de seguridad

porque la diputación foral no puede autoorganizar la seguridad porque es una competencia del departamento y la diputación foral ya tiene establecidas cuáles son sus competencias

en la seguridad institucional y en el órgano de coordinación ya sabe que están ahí y sin embargo usted tiene que hacer una concesión con podemos que habla también de la fiscalidad habla de esto y de lo otro e incluso entra en contradicción entre funcionarios de distinto tipo y de distinta función

con el gobierno y esto es un elemento de irresponsabilidad y usted habla de la flexibilidad laboral

los sindicatos o con los miñones o que no se sabe con quién pero en realidad

es un elemento de organización o la flexibilidad laboral es un elemento de organización que también lo

apruebe un texto pero es un texto que es imposible de llevar a la práctica y usted lo sabe pero ha querido aun así mantenerlo por tener

esto es una provocación yo creo que no pero si usted se irrita y se enfada
yo estoy dispuesto a invitarle a una manzanilla eskerrik asko prieto jauna

señor ruiz de arbulo el tema del horario que usted se centra repito que usted no pone el horario

cuando nos dice el horario es un horario impuesto no es un horario impuesto es un horario

y no ha habido ninguna otra propuesta por parte sindical con lo cual es una propuesta aceptada y es una propuesta es una propuesta aceptada

y además el horario actual o el que

garantiza un buen funcionamiento del servicio

cuestiones subjetivos o personales de preferencias que bueno que hagan que otras personas prefieran otro horario pero desde luego es un horario que garantiza el buen

que amplíe sus fuentes porque o las afine porque

en cuanto a las jubilaciones claro nosotros no hemos negado que va a ver jubilaciones

en los últimos años ha habido veintisiete comisiones de servicios para cubrir las jubilaciones

de forma permanente a través de las nuevas incorporaciones y seguirá habiendo comisiones y servicios pero lo que décimos es que no es la solución adecuada porque ustedes hablan dice el señor ruiz de arbulo de otras formas la ope no es la forma otras fórmulas y cuál es la fórmula no la ha dicho

cuál es la fórmula de cobertura definitiva de los puestos de los funcionarios los concursos de traslados y las ope y la provisionalidad cuando usted habla

bildu qué está proponiendo provisionalidad en la administración cuando en otros debates estamos o estamos oyendo continuamente que eso es el mal el reto

provisionalidad propónganlo pero propónganlo de forma adecuada y por otro lado

qué unidad la comisaría de gasteiz la de laudio la de laguardia

señora garcía en una comisión que me acordé

pues hombre no es lo suyo en cualquier caso lo que les ha unido en esta ocasión no ha habido acuerdo porque ustedes no han querido igual elkarrekin podemos va por otro lado pero

llegar con nosotros a un acuerdo porque se ha condicionado a que siga apareciendo a que siga estando vinculado a las ope de la ertzaintza y ustedes no pueden soportar eso no pueden soportarlo y no ha habido acuerdo

nosotros hemos insistido en que era una condición a la que no se podía renunciar que estuvieran condicionadas a las ope de la ertzaintza y ustedes no lo han podido evitar y en cuanto a soluciones provisionales no sé si el señor ruiz de arbulo también

ope de miñones que la haga diputación no sé yo creo que este debate está trasnochado ustedes

que plantean al final lo que quieren hacer ver es que la sección de miñones va aparte y que es independiente ese debate

en numerosas ocasiones y también lo han tratado en juntas generales ese debate está trasnochado y debería estar superado y en cuanto a las funciones

yo creo que desde aquí digamos qué funciones deben tener los miñones ampliar una ampliación de funciones

su enmienda era delicada y señor arzuaga los miñones

ya sabemos que no quieren ampliar la plantilla de la ertzaintza pero los miñones

y a eh bildu les ha unido no sabemos si por la misma razón o por otra

y cómo se van a cubrir las plazas que lo preguntaba que parece que aunque ahora lo han disfrazado en otras cuestiones en su interpelación decía señora consejera lo único que le pregunto es cuándo y cómo se van a cubrir las plazas

en cualquier caso repetimos reiteramos el compromiso del gobierno vasco de completar el número de efectivos hasta los cien previstos actualmente según vaya habiendo nuevas incorporaciones

recuerda el reciente llamamiento del secretario general de las naciones unidas antónio guterres en relación con el cese de las acciones armadas y el reinicio de un diálogo serio y constructivo

los esfuerzos para acordar una renovación y fortalecimiento del cese del fuego evitando así el retorno al conflicto y protegiendo los logros humanitarios alcanzados en los últimos tres meses insta al gobierno español y al vasco a trabajar con el gobierno colombiano para que adopte medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los grupos y

así como los defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas políticas

de derechos humanos que complemente la función de la oficina en colombia

cuyo papel de vigilancia y elaboración de informes debe reforzarse

muestra su preocupación por la falta de institucionalidad en las zonas anteriormente controladas por las que está ocasionando graves problemas de seguridad para la ciudadanía de esos territorios y dificultades para la